gracias presidenta buenos días lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días egun on quiero en primer lugar

policiales que hoy nos acompañan aquí en el hemiciclo y fuera de la cámara miembros de la

les afecta en su honor en su profesionalidad y en su imagen esta ley podemos hablar de estas leyes esta ley lo será dentro de un rato pero

relación a la proposición de ley del partido nacionalista vasco y el partido socialista que hoy se somete al trámite final quiero manifestar la oposición de mi grupo a la misma

no va a apoyar no va a aprobar una buena ley y ya expusimos una serie de razones en la toma en consideración de la proposición hace unos meses de lo que era nuestra posición en contra de la misma razones fundamentalmente jurídicas pero razones también políticas

votamos en contra de la ley doce barra dos mil dieciséis que esta proposición pretende

parajudicial de investigación de delitos y de vulneraciones de derechos humanos apoyamos el recurso de inconstitucionalidad del gobierno de españa que presentó a la referida

no hemos entendido ni hemos compartido la retirada del citado recurso por parte del gobierno de pedro sánchez cuestión que ha traído a trámite la presente proposición de ley ha sido un profundo error

al tribunal constitucional haber valorado la creación de un órgano administrativo con características judiciales llamado comisión de valoración y la investigación a través de un expediente administrativo de asuntos competencia exclusivamente de los tribunales de justicia desde luego no hemos dicho nunca

que no se deba resarcir a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos todo lo contrario

lo que no puede ser es que una ley autonómica configure un sistema parajudicial que una ley de estas características sirva

sin que haya decisiones judiciales para identificar responsabilidades cito

en nuestro estado de derecho actuaciones del poder público directa y específicamente dirigidas a la investigación criminal si no se realizan bajo la dirección o el control inmediato del poder judicial esta

tribunal constitucional anuló el pasado mes de julio la ley navarra de víctimas por actos de motivación política provocada

y es íntimo el paralelismo entre la ley navarra y entre estas normativas que nosotros tenemos entre manos mi grupo presentó cinco enmiendas a la proposición de ley como lo hizo también en su día la ley doce barra dos mil dieciséis con el propósito de ser enmiendas a la totalidad

nuestra oposición a esta iniciativa legislativa lógicamente no compartíamos

artículos de la proposición o la exposición de motivos o las adicionales que entonces constaban ya que parten de una ley

a nuestro juicio inconstitucional y no modifican sustancialmente el contenido de aquella sino que lo adecuan a unas necesidades más de procedimiento que de fondo lógicamente votaremos a favor de nuestras enmiendas y en contra del conjunto de la proposición de ley además tanto en el proceso

fruto de la retirada del recurso de inconstitucionalidad ha existido grave falta de sensibilidad a lo manifestado por la representación profesional de la policía ellos ya manifestaron su desacuerdo su discrepancia pero parece que la insensibilidad política ha neutralizado su valor esencial de artífices de la democracia esa democracia que hemos ido construyendo

y esta ley conscientemente o no trata de buscar el desprestigio de la policía la policía con sus virtudes y también con sus

sigue siendo uno de los pilares en los que se asienta el estado de derecho y no habrá procedimiento ni estrategia que impida conocer lo que la sociedad vasca y española les debe

lo contrario sería una gran indignidad y solamente un juez puede decir qué cosas se hicieron mal

administrativa establecida compuesta por psicólogos o médicos o historiadores o algún jurista no juez para conocer

o resumir los hechos etcétera estas cuestiones están reservadas a los jueces cuando se presumen delitos o vulneraciones de derechos humanos están reservadas al poder judicial para los fines que persigue esta ley

serían necesarios otro tipo de reformas legislativas que afecten al poder judicial

incluso al código penal o a la protección del derecho al honor protección del derecho a la defensa pero esta ley no puede tener un pase

en un texto que por vía administrativa trataba de resolver asuntos de competencia judicial y como decía antes con esta regulación lo que sí está garantizado es un paso más en el desprestigio la guardia civil y la policía nacional ya que les pone bajo sospecha en un proceso en el que no podrán defenderse ni personal ni colectivamente o en el que solo cuenten testimonios que les lleven a una identificación

una estrategia contra su derecho al honor que ya inició el gobierno vasco con la elaboración de un informe sobre torturas entre mil novecientos sesenta y dos mil catorce

sin la existencia de ninguna sentencia judicial por tanto hablamos parece que se está hablando

contextualizar el terrorismo de eta precisamente contra un colectivo que tuvo un papel clave en la lucha contra el fanatismo y que lo sufrió de una manera muy directa no podemos olvidar los trescientos sesenta y ocho agentes de la guardia civil

para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado nuestro firme reconocimiento

quieren desacreditar su trayectoria profesional debilitando los valores de nuestra democracia en resumen

que se pretenden introducir en la ley esta continuaría desde nuestro análisis incurriendo en inconstitucionalidad por dos tipos de razones por una parte porque la ley doce barra dos mil dieciséis atribuye a la comisión de valoración un carácter paralelo al jurisdiccional

y en particular sus artículos ciento diecisiete y ciento veintidós

como un poder del estado lo que implica dos consecuencias la primera que la función jurisdiccional es exclusiva de los jueces y la segunda que el estado tiene la competencia exclusiva

y por otra parte asimismo la ley doce barra dos mil dieciséis es susceptible por esta vía y la aplicación

artículos y de los artículos que surgirán modificados después de la aprobación de esta proposición de ley es susceptible de vulnerar a través de su aplicación los derechos fundamentales protegidos en las artículos dieciocho

veinticuatro de la constitución española

de inocencia y la tutela judicial efectiva efectivamente señora presidenta como ya lo hemos explicado ya lo hicimos también

esta proposición de ley no compartimos la ley de la que arranca esta proposición de ley desde luego ha sido un error

el actual gobierno de españa el recurso de inconstitucionalidad votaremos en contra de esta proposición de ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

el grupo socialista quiere continuar en el pleno de hoy con una tarea inacabada la tarea de reparar a quienes hayan sido desasistidos por los poderes públicos cuando se han vulnerado sus derechos la tarea de fortalecer el estado de derecho que tras conseguir vencer al terrorismo sin tener que ceder nada a cambio

de reparar los fallos que haya podido incurrir y la de hacerlo además desde el escrupuloso respeto a la separación de poderes desde la garantía de los derechos de quienes han sido injustamente violentados y la de los derechos al honor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

expresamente avaladas por el tribunal constitucional y la de hacerlo además desde el acuerdo entre dos gobiernos el gobierno de españa y el gobierno vasco como se hizo en el pasado con el decreto por lo tanto es una satisfacción volver a la senda del acuerdo y esto es lo que contiene

ninguna otra interpretación ni ninguna otra lectura los socialistas llegamos a este punto por convicción democrática y sobre todo por compromiso político

pero llegamos también tras haber explicado con claridad nuestras intenciones a las víctimas a las que se refiere esta ley

sobre su alcance o las intenciones y a los colectivos policiales a los que algunos han dado argumentos para estar preocupados por su honor y la presunción de inocencia

porque como consejera me correspondió explicarles desde el inicio de este proceso el del decreto del año dos mil once que hoy permite que haya ciento ochenta y siete personas reconocidas que ni el gobierno ni el parlamento van a satisfacer su demanda de justicia que no es nuestra competencia pero sí lo es la reparación y reconocimiento con las víctimas del terrorismo que nunca han reclamado venganza

no quede diluido en una supuesta teoría del conflicto y en la confrontación

con representantes policiales que temen que la aprobación de esta ley pretenda borrar el compromiso democrático de los agentes que han velado por la protección de todos y que han conseguido

y en todos estos colectivos detectamos recelos y dudas entendemos todas pero nuestra labor como partido es que esas dudas esas inquietudes las dejemos zanjadas a través de una ley clara como es esta de hoy que refuerza su seguridad jurídica

para la investigación de hechos delictivos establece que cuando estas investigaciones están desvinculadas del proceso penal y que su función es otra no la de su capacidad punitiva es decir lo que busca la investigación no es sancionar

hoy expresamente caben perfectamente en la constitución seguridad para las víctimas del terrorismo porque esta ley expresamente rechaza la teoría del conflicto seguridad jurídica para las víctimas objeto de esta ley porque ratifica la finalidad

seguridad jurídica para los profesionales policiales porque esta ley descarta expresamente que nadie pueda pretender sustituir a los tribunales

resarcitoria a las víctimas debe ser ejercida fuera del proceso penal y desconectada de cualquier pretensión de castigo al eventual responsable de los hechos pero es que además de todo esto que hacemos lo hacemos con tres referentes políticos el acuerdo unánime de este parlamento en el año dos mil once que instaba a los poderes públicos a establecer las medidas normativas precisas

de estas víctimas por cierto señor barrio dónde está el partido popular que votó a favor de esa iniciativa política en esta cámara el decreto del año dos mil doce que reconoció a quienes vieron vulnerados sus derechos antes de la aprobación de la constitución sin que tampoco ningún grupo presentara objeción alguna y sin que ningún tribunal

esa actuación dónde está el partido popular con quien yo acordé ese decreto el acuerdo entre los gobiernos de euskadi y españa en relación a aquel decreto a cómo encauzar esta ley dónde estaba el partido popular cuando tanta falta hacían los acuerdos entre su gobierno y el gobierno de euskadi para avanzar

y además los socialistas lo hacemos desde una convicción ética

para asesinar extorsionar ni segar una vida ni atentar contra la integridad de nadie

ni con la excusa de eta y con la misma firmeza décimos

no es excusa para que quienes padécimos a la banda terrorista reconozcamos la injusticia de cualquier vulneración de derechos

la ley que vamos a aprobar teniendo en cuenta la doctrina del constitucional las dudas de este tribunal tenía sobre seis cuestiones concretas de nuestra ley y los criterio que ya había establecido sobre alguna otra normal como la navarra y señor barrio no se parecen en nada

un camino equivocado y que ha dado pie a que el constitucional haya aclarado determinadas cuestiones

porque la ley anulada en navarra no nos sirve como ejemplo por mucho que se empeñen algunos no nos sirve que ponga como ejemplo lo que ya no está además vigente si quiere

por qué hicieron una norma que han asumido ahora que no satisface a las víctimas

han asumido el camino que emprendimos aquí en euskadi pero no puede ser argumento para oponerse a esta ley simplemente porque no son iguales y también

porque a diferencia de lo que ocurrió en navarra en el caso de nuestra ley de todo lo que fue recurrido en su momento tan solo hubo seis cuestiones puntuales sobre las que se mantenían en dudas y son las seis que hoy dejamos claras

lo que estamos debatiendo hoy no es ni la motivación ni el objeto de la ley como parece pretender el pp de ahora sino unas cosas concretas que despejan las dudas planteadas

el estado de derecho la constitución que impide tratos degradantes hacia las personas el estatuto que nos ofrece instrumentos

estado de derecho constitución y estatuto que otros se empeñaron en denigrar y abatir

cuáles de esas cuestiones no gustan al partido popular no le gusta la comisión de valoración ni sus funciones porque en esto el constitucional ya nos ha hablado con claridad ya nos ha dicho que la investigación penal de hechos delictivos está sujeta a reserva jurisdiccional pero que es posible la constitución

el resarcimiento de la condición de la víctima a efectos resarcitorios

en los que esto ha ocurrido ya en muchos ámbitos por ejemplo los civiles y ahí queda claro que el trabajo de esa comisión a los responsables de los posibles delitos sino el resarcimiento de las personas que han sufrido las consecuencias de esos hechos o acaso lo ha hecho la comisión que ha permitido reconocer a ciento ochenta y siete víctimas y que fue respaldada por el partido popular qué ha cambiado señor barrio

es algo que el constitucional no ha puesto en duda pero el partido popular la verdad es que lleva una racha interesante en cuestionar todas nuestras competencias y hoy parece que también cuestiona las que tenemos en materia de desarrollo comunitario en materia de sanidad o en materia de asistencia social porque es en esas en las que se basa esta ley

por qué siembra sospechas sobre la posibilidad de un recurso quienes se sientan afectados por cualquier resolución van a poder recurrirla como cualquier otra decisión administrativa así que dejemos ya las sospechas y los intereses ocultos que no los hay dejemos

como instrumento de acción política si somos defensores de los derechos humanos que no haya medias tintas si nuestra apuesta por el sistema democrático y el orden constitucional es firme no demos pie a quienes cuestionen su fortaleza

violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los poderes públicos los socialistas rechazamos que se marquen distancias con las vulneraciones que hayan podido cometerse

a las modificaciones legales que hemos propuesto que buscan fortalecer nuestro estado de derecho que buscan acomodo en la doctrina constitucional y en nuestras competencias
es lo que votamos hoy y a eso debiéramos de ceñirnos en el debate muchas gracias eskerrik asko mendia anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

egun on guztioi voy a tratar de explicar

imperfecta en la que la amenaza constante del tribunal constitucional en cada paso realizado ha condicionado la exploración de senderos jurídicos seguramente más justos y humanos nire

eta han esan nuen bezala gaur ere esaten dut han esan nuen este tipo de leyes van a permitir sanar físicas y psicológicas de todas las personas que hemos sufrido y sobre todo van a poder prevenir futuras violaciones de derechos humanos

y sigo pensando aquello que dije necesitamos una ley terapéutica

los caminos de la sanación social tenemos que seguir trabajando para que el principio de igualdad de derechos de todas las víctimas

eso significa que todas deben gozar del derecho a la verdad a la justicia a la reparación y las garantías de no repetición y como sabemos

no se cumplen esos derechos incluso aunque exista una verdad judicial durante décadas determinadas personas investidas de autoridad lejos de ser los garantes de la ley se convirtieron en transgresores de la misma y del cuadro de valores

disponiendo asimismo de efectivas posibilidades para entorpecer cualquier investigación y con la modificación de esta ley no es simplemente

ese derecho a saber la verdad sino que directamente se prohíbe no cabe negar los hechos los hechos que ocurrieron por diferentes que sean las interpretaciones que se hagan de esos hechos pero esas interpretaciones no deben empañar una verdad

y yo me pregunto cómo reforzar los mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las victimas obtener esos derechos de verdad justicia y reparación mediante procedimientos oficiales justos y accesibles aprovechando ya sea el marco internacional

nuestro parlamento autonómico por supuesto a mi modo de ver el mejor espejo

es el derecho internacional de los derechos humanos sabemos que el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos es

reparadora y reconciliación la verdad no se tiene que quedar en el círculo más íntimo de las víctimas sino que tiene que ser reconocida

el derecho a la justicia implica en primer lugar la investigación y en segundo lugar el derecho

las medidas para evitar la impunidad ante las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y es que la impunidad tiene efectos devastadores para las víctimas de violaciones de derechos humanos

que el derecho a la reparación no va a solucionar todos los problemas ciertas secuelas de graves violaciones de derechos humanos son irreparables tanto en su dimensión individual como colectiva en ocasiones las heridas son de naturaleza tal que a lo máximo a lo que se puede aspirar es que las victimas aprendan

generalmente los gobiernos apuestan por un periodo de tiempo corto y limitado

ponen el acento en conocer la verdad y en que se haga justicia los programas de reparación han de concebirse como procesos continuos y no como un momento concreto en el que se llevan a cabo determinados actos simbólicos y se entregan a las víctimas algún tipo de ayudas

a pesar de que estos tres derechos verdad justicia y reparación son independientes y admiten un cumplimiento separado hoy en día

más como elementos interrelacionados y tienen que estar necesariamente presentes en los procesos en los que se trata de superar

plagado de violaciones de derechos humanos una combinación de estos tres derechos puede que sea lo más adecuado para transitar por el siempre camino de la reconciliación tras años de ausencia de respeto a los derechos humanos

es cierto que cada víctima es un mundo y cada tipología de vulneración de derechos humanos particular pero si algo aprendimos

el mismo derecho a ser reconocidas a su dignidad y a la reparación y hoy se da una situación

en ese reconocimiento las victimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita siguen estando en una situación

hemos actuado con responsabilidad y aunque no estábamos para nada de acuerdo con la interpretación restrictiva del tribunal constitucional nuestras enmiendas

por lo que no entendemos muy bien que no se haya aceptado por los partidos que sustentan al gobierno ninguna

ustedes siempre nos dicen que el marco jurídico

y que no tenemos competencias para legislar de otra manera ya que esa competencia es del estado pero yo me pregunto qué ocurre cuando un estado

para negar aquello que ha firmado en un tratado internacional hace caso omiso y no respeta sus propias leyes y es que el tribunal constitucional de forma insidiosa y sibilina

al impedir la igualdad de derechos de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos si hacemos un balance de las vulneraciones de derechos

observamos que cuando quien comete el delito lo realiza en nombre o amparado por el estado las consecuencias jurídicas no respetan

es decir no respetan sus propias leyes actuando de forma injusta

debemos revertir esa situación por eso estamos en política para buscar fórmulas alternativas como las que nosotras hemos intentado establecer con las enmiendas que ahora se nos rechazan por qué he explicado todo esto

la modificación de la ley que hoy se va a aprobar es una ley que ya era incompleta en su origen

que se hizo no con una vocación de reparación integral sino de apoyo parcial y con lo que buenamente se creía que se podía

y que lejos de buscar esa sanación del conjunto de la sociedad solo ofrecía una verdad con minúsculas

administrativa una verdad como en pequeñito y hoy esa ley limitada se modifica

de esta manera pero aún así es una ley es la única ley que tenemos muchas de nosotras y ese poquito de reparación y de verdad que nos ofrece representa tanto para quienes tuvimos

durante tanto tiempo que ningún juego parlamentario debería ponerlo en riesgo por eso elkarrekin podemos

ojalá pueda esquivar el peligro de ser recortada más aún o incluso tumbada por el tribunal constitucional por todo ello

que esta ley no es la solución que las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en un contexto de emoción política necesitan y además ustedes ya lo saben

considero necesario seguir trabajando buscando el verdadero reconocimiento y reparación integral para todas las víctimas indistintamente

solo me queda recordarles que les dejamos algunos deberes por hacer

por supuesto cuenten con este grupo para trabajar para recuperar la justicia democrática y disminuir el sufrimiento eskerrik asko

mi desprecio más rotundo más absoluto para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que están haciendo infecto asqueroso para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos

total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado para mí ustedes son los que protestan porque hubo un juicio en núremberg
para mí ustedes isiltasuna mesedez son los que protestan porque hay una corte nacional de justicia isiltasuna mesedez para mí ustedes

para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos esto es

isiltasuna mesedez mesedez isiltasuna está en el uso de la palabra

lasaituko gara mesedez por favor el que está en el público

si quiere permanecer en el pleno que se siente ez daukazu hitza

erabiliko bada ere goitizen mingarri hori no sois víctimas de abusos fue algo más que un mero abuso lo que vosotras sufristeis y hago un llamamiento también a medios de comunicación a comentaristas políticos a creadores de opinión a tertulianos a partidos políticos a que no califiquen a esta ley

sino que la llamen por el nombre que tiene ley de víctimas de vulneraciones de derechos humanos a las leyes se les pone sobrenombres normalmente para ridiculizarlas y es lógico que lo hagan quienes se oponen a ellas pero me resulta extraño que sean los propios proponentes los que impulsan esta ley

de lo que ustedes sufrieron de esos tratos vejatorios de ese terrorismo de esas vulneraciones gravísimas de derechos humanos que además se tienen que reconocer así en sí mismos por la importancia que tuvieron en sí mismos y en comparación con lo que sufrieron otras víctimas en sí mismos porque me niego a considerar que las torturas por poner un ejemplo

el sufrimiento que ustedes sin duda han sentido

no puedo entender que las circunstancias odiosas que se producen en la muerte y

o el caso de mikel zabalza fuera un mero abuso pero tampoco lo entiendo en comparación con el trato que se le da a otras víctimas en cuyos caso sí un terrorismo sin paliativos el mismo hecho sufrido por otras víctimas el mismo asesinato cometido por un autor en este caso estatal por un policía

un mero abuso y lo que quiero decir es que hay que reconocerles a ustedes en toda la entidad y en toda la profundidad lo que ustedes sufrieron izan ere lege honekin daukagun

ohorea y por eso décimos que en esta reforma parece haber pesado más la demanda de reforzar el honor del victimario que la dignidad

pedir absolutamente todo su derogación que no se tenga en consideración y que por lo tanto no haya ningún tipo de reparación y de reconocimiento a las víctimas y aquí les tenemos grupos que no quieren que se reconozcan a las víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos perpetraron

su total impunidad se han reunido además con todos los grupos de esta cámara menos con eh bildu con lo cual me siento además orgulloso

en comisión se aprobó con el voto mayoritario derogar

porque nos explica que la acreditación de vulneración de derechos humanos no podrá desconocer lo ya resuelto de la jurisdicción penal esto nos da tres problemas que quiero que queden encima de esta mesa porque este debate

pero de esto no hemos hablado el primer problema que nos

separar se están mezclando la jurisdicción penal con el orden administrativo

mezclando la verdad judicial que se debe imponer en sede penal para imponer un castigo con el reconocimiento administrativo para procurar reparación

una mala técnica segundo porque esto va a dificultar el trabajo que tiene que hacer la comisión de valoración

el primero el que haya muchas víctimas que se van a quedar fuera de reconocimiento todas aquellas víctimas

o los considere accidentales o tal vez lícitos o legítimos y por otro lado si la comisión se atrevería contradecir lo que dice una decisión penal tenemos asegurado el conflicto estas asociaciones van a recurrir a los tribunales van a ir al contencioso administrativo para recurrir las decisiones de la comisión de valoración precisamente para que se haga lo que ellos quieren que es que no haya ningún tipo de reconocimiento y reparación a estas víctimas horregatik mantenduko dugu

las enmiendas planteadas por el partido popular solo buscan vaciar el contenido de la ley hablemos claro

y cuando el señor barrio dice que buscamos la creación de un sistema parajudicial falta a la verdad y lo hace conscientemente

sabe que planteamos un órgano de expertos para valorar los expedientes y acreditaciones que las y los ciudadanos solicitantes de reconocimiento y ayuda

valorar no es investigar y menos juzgar no retuerza la realidad señor barrio averiguar y fijar hechos delictivos le corresponde al poder judicial

usted sin embargo retuerce los hechos para tratar de evitar en la práctica la actuación de atención social que pueden y deben desarrollar las administraciones públicas

de eso se trata y la ley lo deja claro y usted lo sabe y sabe que asumir las enmiendas del pp supondría anular cualquier capacidad a la ley

han sido muchos los debates sobre este tema pero se lo voy a volver a decir previsiones como las que establece esta ley están aceptadas literalmente palabra por palabra en la práctica totalidad de normas para la reparación y reconocimiento de víctimas estatales o internacionales para empezar lo reconoce literalmente la ley de víctimas del terrorismo del congreso de los diputados en su artículo tres bis la ley veintinueve barra dos mil once establece

que ese derecho viniera reconocido mediante sentencia firme o en un segundo lugar

se pueda acreditar la condición de víctima ante la administración por cualquier medio de prueba admisible en derecho se lo repito cualquier medio de prueba admisible en derecho y esa es precisamente la expresión que ustedes pretenden eliminar con una de sus enmiendas pretende eliminar algo que recoge literalmente la ley de víctimas del terrorismo

esto es tratar de evitar en la práctica el reconocimiento a las víctimas pero no solo esta ley el artículo dos del convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos

graves daños en su salud como resultado directo de un delito intencional de violencia y añade que esa indemnización se concederá incluso si el autor

aceptando su argumento señor barrio las víctimas por ejemplo de la violencia machista

pública de las administraciones públicas a falta de sentencia firme y esa

pero también lo reconoce el derecho internacional humanitario más en concreto

de naciones unidas sobre los derechos de las víctimas en cuyo artículo nueve dice literalmente una persona será considerada víctima

aprehendido juzgado o condenado por lo tanto la pregunta al partido popular sigue siendo estas víctimas existen o no existen y si existen

para repararlas hasta el momento lo único que han hecho es tratar de impedir por todos los medios eso sí el reconocimiento y reparación a estas víctimas

una ley debe pasar un sistema de controles y contrastes una ley se somete al principio de contradicción

esta ley se introduce en un territorio complejo y difícil afecta a heridas del pasado lo sé

estos años en la ponencia de memoria y convivencia qué les voy a decir a ustedes que todavía les está costando tanto reconocer que lo que pasó fue injusto pero hablar de cepillado y hacerlo de forma despectiva como hace usted implica desentenderse de la realidad ustedes critican y se abstienen ustedes se ponen estupendos elevando el listón de la exigencia hasta donde saben que es inviable

que otros asumimos el impulso a la ley juegan a seguro porque saben que otros

pero ustedes se ponen estupendos aquí aquí sí pero en el parlamento de navarra no tan estupendos allí ustedes eh bildu y podemos o los podemos de navarra también votan a favor de una ley que se parece a esta como dos gotas de agua y que tiene las mismas cautelas respecto al derecho al honor que nuestra ley han votado sí allí e incluso a algunas de las enmiendas del partido socialista presentan los contenidos de esta ley defendiendo los mismos argumentos que hoy estoy utilizando yo aquí este comportamiento incoherente inconsistente y yo diría diletante es la prueba definitiva de la falta de sinceridad de las palabras de hoy

he reconocido que estamos recorriendo un camino difícil esta ley está recorriendo un camino difícil estamos tratando de garantizar su plena seguridad jurídica porque las víctimas lo merecen y lo merecen ya

esta es una buena ley lo era antes y lo es ahora y mientras ustedes se abstienen esta ley ha obtenido el respaldo de importantes juristas y organizaciones internacionales

para la promoción de la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición

gracias señora presidenta miren nunca en la historia de este parlamento se ha insultado al público a las personas que vienen a esta cámara a atender a seguir sus debates

hemos visto tal capacidad de insulto de menosprecio que hoy y desde luego nosotros lo que sí que tenemos que decir es que

a la representación de uno de los pilares de la democracia de nuestra policía nacional guardia civil

hoy en esta cámara nunca en la historia de este parlamento se ha insultado de esa manera y desde luego lo que tenemos que hacer fundamentalmente en este momento

es condenar los insultos y las graves e injuriosas palabras

de bildu y que conforman como yo decía en mi primera intervención esa estrategia que se conseguirá

de desprestigiar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a la policía autónoma ese es el fin que lamentablemente una ley mal hecha

mire señora mendia a mí no me ha convencido a mí no me ha convencido yo creo que ustedes se han equivocado

desde el principio con esta regulación y lo han hecho de una manera aumentada ahora acordando una retirada

por fines políticos de una cuestión que necesitaba una resolución judicial clara y el tribunal constitucional era la mejor fórmula para saber dónde estábamos cómo nos encontrábamos y cuáles eran las claves de esa ley la ley doce barra dos mil dieciséis que desde luego proposición de ley que ustedes presentan no ha ayudado ya sabemos que esta ley no presenta no busca directamente identificar presuntos culpables pero sí y usted lo sabe logrará poner

a un colectivo de personas perfectamente identificables por la investigación de la comisión de valoración y por su informe sentencia

a la culpabilidad de personas y eso lo sabe usted perfectamente después

de esa comisión de valoración está bien claro que esa sentencia ese informe sentencia no será en principio de culpabilidad directa contra persona alguna

tras la resolución del expediente a otra persona una serie de derechos económicos

maltratado en unas dependencias judiciales

a una hora h en un lugar cincuenta alguien fue maltratado y en consecuencia alguien fue responsable vale y todo

administrativo sin jueces sin fiscales sin abogados defensores ni siquiera sin imputados sin imputados es decir

pues ni más ni menos que los que la comisión de valoración dictamine en la resolución final

está claro señora mendia hay que hacer un análisis de cómo va a funcionar el procedimiento en esa comisión de valoración a través de la recogida de testimonios de esas pruebas

va a ser declarativo de culpabilidades y de identificación de responsabilidades eso lo sabe usted perfectamente señora zabala una ley terapéutica pues eso será una ley

pero una ley terapéutica no crea un sistema parajudicial

y una ley autonómica no hace que los derechos fundamentales que determinadas cuestiones puedan ser reguladas con todas las garantías y esto lo es por eso nosotros que el tribunal constitucional la analice no haber aprobado este tipo de iniciativas y que hubiese sido otro el órgano el congreso de los diputados otra serie de sentencias

orgánicas ley de enjuiciamiento criminal es decir la propia constitución incluso determina una serie de cuestiones pero no una ley autonómica en ese sentido

y señor iturrate tribunal constitucional y navarra usted dice el paralelismo que hay es decir es que el tribunal constitucional dijo que no son posibles en nuestro estado de derecho por el paralelismo entre la ley navarra

no son posibles en nuestro estado de derecho actuaciones del poder público directa y específicamente dirigidas a la investigación criminal

y las investigaciones de la comisión de valoración van a ser investigaciones criminales lo saben ustedes lo saben todos ustedes y eso no lo puede hacer una comisión de valoración muchas gracias

dar mi reconocimiento a los colectivos que con su trabajo su dedicación han facilitado que estos señores hoy les insulten

en favor de la democracia española y mi desprecio político a quienes hoy

es de las víctimas a quienes peor favor habéis hecho hoy

es a las víctimas que esta ley pretende resarcir y reparar es una auténtica vergüenza lo que hoy se ha hecho desde esta tribuna y además creo que

he entendido que podemos hablar con libertad los parlamentarios pero desde luego no podemos establecer un debate con quienes asisten como invitados

a las tribunas de esta cámara y que además están indefensos porque no pueden tomar la palabra hoy hemos asistido a un acto lamentable de utilización política

y un antzerki por parte de varios grupos en esta cámara yo la verdad es que primero decir que

española porque la democracia española la única

que ha padecido en todos estos años lamentablemente es la existencia de una banda terrorista

con apoyo de un partido político y que a día de hoy todavía estamos en esta cámara con un grupo que no es capaz de reconocer la injusticia de matar de secuestrar y de extorsionar en el pasado por lo tanto esto es lo que estamos asistiendo hoy todavía y vemos que queda mucho trabajo por hacer y además creo que nos hemos olvidado y los que hemos estado en la ponencia de memoria de esta cámara en esta legislatura hemos escuchado a las víctimas y las víctimas lo que principalmente

reconocimiento y reparación y es lo que esta ley tiene que pretender señor carmelo barrio mire

ha establecido usted el que más ha lanzado más tinta y más dudas sobre la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

usted y yo estamos de acuerdo creo que en lo esencial usted y yo estamos de acuerdo en que hay que reconocer a las víctimas del terrorismo y las víctimas de vulneraciones de derechos humanos

es que cuando hay que hacer la aprobación de esta ley para iniciar el camino del reconocimiento en el segundo periodo es donde ustedes empiezan a tener los problemas pero creo que en lo esencial estamos de acuerdo y por eso creo que debieran ustedes de reconsiderar su posición política y sigo insistiendo usted es el que más nebulosas de culpabilidad

la ley y la comisión de valoración la del decreto y la que ponga en marcha la aprobación de esta ley es

española y de las leyes internacionales y se dan multitud de casos fuera de los procesos penales de investigaciones que van

en casos por ejemplo de accidentes ferroviarios de accidentes de aviación civil y hemos tenido casos recientes en españa de ello y son comisiones técnicas de expertos técnicos cuya única finalidad es establecer el esclarecimiento de los hechos para poder resarcir y establecer quiénes han sido víctimas de esos accidentes

lógicamente y ahí está el procedimiento establecido en la ley de la comisión de valoración porque una administración pública tiene el deber de hacerlo con garantías jurídicas uno no puede llegar a una ventanilla decir que es víctima y ser reparado económicamente y resarcido y tener acceso a unos beneficios sanitarios etcétera por lo tanto

por lo tanto no manipulemos otra cosa es que ustedes no quieran aprobar esta ley no quieran avanzar por el camino que comenzaron a hacer

y que yo acordé con el partido popular y acordé con el gobierno del partido popular y ustedes ahora parece que les gusta el decreto entonces no les gustaba tanto

creo que aquí nos hemos olvidado hoy de la centralidad de a lo que estamos que es al reconocimiento de los sufrimientos injustos al reconocimiento de las víctimas a la deslegitimación del terrorismo a la puesta en valor de las instituciones democráticas y del estado de derecho y a lo que nos diferencia siempre a los demócratas que somos capaces de depurarnos a nosotros mismos y señora zabala representante del grupo elkarrekin podemos

hay muchos en esta cámara presentes y en el pasado que pudieran hacerlo a título personal como víctimas porque en este país ha habido muchas víctimas pero aquí venimos a buscar la reparación y el reconocimiento con esta ley no a hacer declaraciones personales a hacer un trabajo en representación de los ciudadanos que nos traen a estos escaños a eso venimos y para eso lo hacemos

zenbat y sí es cierto aquí no venimos a hablar de nosotros de lo que hemos sufrido y he intentado no hablar de mí

de treinta y cinco años de su vida y quisiera recordar un párrafo de la sentencia del magistrado joaquín jiménez que decía a lo largo del año mil novecientos ochenta y tres

la idea de aceptar la realización de acciones violentas

como vía para acabar con ellos de lograr la detención en francia y el traslado a españa a fin de obtener información

hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fuesen descubiertos valiéndose de algunos de los miembros de las fuerzas de seguridad

eta orain carmelo barrio jauna

ni víctimas sin memoria es una forma de decir que no se pueden hacer políticas de memoria que no partan de la centralidad del testimonio de las víctimas

de ellas y de otras víctimas ni puede ser que tengamos

y hoy lo que se debate es esto segundo si las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos

los malos tratos tienen memoria o no tienen memoria ustedes verán si quieren continuar

negándosela yo ni mi grupo jamás negaremos

que otras personas de esta cámara han padecido porque tan injusto

y es que la memoria es incómoda como lo acabo de decir es políticamente incorrecta

ya que no se enfrenta con esos demonios y esas vergüenzas del pasado un pasado al que en muchas ocasiones se le han otorgado interpretaciones excesivamente complacientes

insostenible yo creo que a veces hay que intentar buscar formas de esquivarlo

de que ya no interesa a la ciudadanía que ya no es tan urgente como hace unos años

arriba pero sobre todo de arriba abajo esa es la más importante esa es la que nos hace falta y esa es la que todavía creo que no estamos del todo dispuestos

señora mendia puedo hablar en libertad porque es lo que he intentado hacer

la libertad para hablar la otorgan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado les tengo que agradecer de ello ellos deciden si puedo hablar o no puedo hablar

punto de vista si esa es su interpretación de lo que es la democracia española efectivamente yo no la quiero es una vergüenza

en igualdad de espacio al menos en igualdad de formas

con palabras gruesas porque el hecho que aquí se ha producido hoy me obligaba a ello

por conocerlos pero sí han sido palabras indignadas porque me ha parecido que

quiero responder con tranquilidad al señor carmelo barrio porque no es problema de forma no es un problema de técnica jurídica como él parece traer

que la justicia ha estado absolutamente ausente para con estas víctimas y así lo ha demostrado además nueve sentencias del tribunal

investigar gravísimas vulneraciones de derechos humanos su problema no es el de la técnica jurídica su problema no es de forma su problema es de fondo y

y parece que para ustedes si hay otras violencias que van aflorando pues ese pierde fuelle pierde agua parece que la violencia de eta se descontextualiza y parece que ustedes prefieren hacer un relato sin verdad sin víctimas sin todas las víctimas sin esas víctimas que le son molestas y

pero no es el que va a salir de esta cámara a la señora

horrela izango da y no es que nos pongamos estupendos es que nos ponemos tal vez rigurosos que nos ponemos ambiciosos y que no nos gusta que algunas víctimas por esta reforma se vayan a quedar fuera y nos tocará tal vez traer otra reforma a esta ley para que esas víctimas que se vayan quedando por el camino las

a recuperar y las traigamos a este debate le digo en serio hubiese preferido llegar a un acuerdo con usted hubiese preferido no tener la posición que ahora me reserva usted que es la del ya lo dije

a un acuerdo en el cual pudiera decir no ya lo dije sino lo resolvimos con responsabilidad lo que pasa es que usted venía de otro juego venía de madrid

cámara para después intentar pasar la reforma que firman allí pues veamos con qué votos

pues ustedes ya obviaron el llegar a cualquier tipo de acuerdos o llegar a cualquier tipo de debate incluso con nosotros algo que me parece incoherente la señora idoia mendia dice que la ley de nafarroa

que le queda en este turno espero que me lo explique vuelvo a decir

de nuestro pasado más reciente y esto se ha parecido en varias ocasiones a más a una catarsis o a una

con intenciones pseudosanadoras que a una sesión parlamentaria a ver si conseguimos reconducir

de lo complicado de la tarea que estamos acometiendo especialmente desde la ponencia de memoria y convivencia a la que

unos y otros están intentando mover desde fuera señor barrio la ley navarra

es la que se aprobó el día veintiuno de marzo del dos mil diecinueve o sea hace veinte días

no se ha pronunciado todavía usted hablaba pero yo digo que son

y la ley del parlamento navarro aprobada hace escasos veinte días a la que usted ustedes el partido popular la derecha navarra también votó en contra porque se siguen negando a reconocer la existencia de estas víctimas ustedes

porque no hay ningún sistema parajudicial y la ley lo dice expresamente no busca investigar los hechos

no busca señalar victimarios y es una de las tareas que quedan pendiente a los poderes del estado hacer frente a la impunidad que ha estado sobre sí pero los poderes del estado que han detentado y ostentado ostentado y

y es una tarea pendiente no pretendemos eso mire de hecho

a día de hoy ya ha reconocido y reparado a ciento ochenta y siete víctimas a través del decreto

se ha lesionado algún derecho se ha señalado algún culpable se han vulnerado los derechos de alguien ha habido investigación criminal o suplantación de jueces y tribunales

insisten en algo que es mentira y todo porque prefieren retorcer la verdad falsear la realidad con el único objetivo de ocultar su falta de reconocimiento y su falta de compromiso

y su falta de compromiso con acabar con la impunidad que hay en torno a estos delitos

señor arzuaga los cambios introducidos no alteran para nada el universo de las víctimas el artículo dice que no se podrá desconocer el contenido de las resoluciones judiciales ya dictadas claro de sentido común la comisión debe tener en cuenta todos los datos disponibles

en las dos intervenciones se le ha puesto en rojo el reloj le voy a

hace veinte días complicado con muchas cortapisas con muchas limitaciones pero sí que nos impusimos la tarea de intentar sortear los obstáculos que el tribunal constitucional

en la cual el objeto de esta ley ni de la anterior siquiera es en ningún caso imputar delitos concretos a nadie en concreto

que al mismo tiempo ha provocado que esa persona a la que se han vulnerado sus derechos tenga la condición de víctima y tenga el derecho al reconocimiento y la reparación cuesta respirar

ley anterior y es lo que busca esta ley y también desde la perspectiva de que en todo momento estamos hablando de un proceso administrativo de un proceso administrativo que no tiene nada que ver con la jurisdicción penal

en esta y con todas las reservas y con todas las cautelas que hemos adoptado creo que a nadie se le escapa que queda bien en evidencia de qué estamos hablando eh bildu va a votar a favor de esta ley también con sus reservas como hacemos nosotros porque desde luego esta ley no nos satisface como tampoco satisface a las víctimas en teoría a las que podía beneficiar esta ley decía en anteriores intervenciones que es agridulce porque tiene el objeto y la tarea que acometimos a la hora de elaborar esta ley que es necesaria y es necesario no cerrar puertas le suena

la puerta quede entornada y todo lo que suponga avanzar es positivo le suena se parece bastante

hoy lo que hemos visto aquí es una estrategia barata bastante barata bastante impostada para monopolizar la imagen y protagonizar una sesión

se habían puesto de perfil se habían puesto de perfil porque era mucho más cómoda para ustedes que lo hiciesemos nosotros y nos tendrán que explicar por qué se ponen de perfil aquí y no se han puesto de perfil

lo que dice el artículo ochenta y uno y ochenta y cinco del reglamento de esta cámara solicito

una manifestación el artículo ochenta y cinco señala que en cualquier momento del debate el parlamentario que quiera

expresa muy concreta que tiene que ver con los artículos ochenta y tres ochenta y cuatro y siguientes del reglamento básicamente decir que no hemos encontrado en todo el reglamento ningún artículo que permita censurar las palabras de un parlamentario y que sí hemos encontrado en el reglamento

las personas invitadas interrumpen el orden de la sesión lo alteran insultan a parlamentarios eso se tiene que recoger en el acta de cara
a hacer acciones legales aquellas personas eskerrik asko goirizelaia anderea pedimos expresamente

que se han colado demonios en este parlamento yo creo que se han colado elementos incontrolados que han actuado con total impunidad y que si lo hacen hoy aquí en este parlamento qué no harán o qué no habrán hecho en los calabozos y en otros sitios oscuros

esa también es la historia de este país eta nik eskatuko

eta esaten du sententzia honek que este tipo de legislación no crea derecho

y que se está hablando de cláusulas predispuestas de cláusulas predispuestas en la contratación de nada más y que por tanto es totalmente legal y totalmente lícito que la administración pública

esaten duena da que la contratación no se tiene que valorar como un fin sino como un instrumento para desarrollar otras políticas públicas en ámbitos como el medioambiental el social

pymes etcétera eta habla de incluir de manera transversal criterios sociales y medioambientales eta para colmo dice

establece iniciativas para la incorporación a los procesos de contratación pública

para la inclusión de cláusulas sociales y de criterios medioambientales eso es lo que dice el señor azpiazu por tanto se supone que hay una voluntad importantísima

jaurlaritzak emandako datuen arabera la recaudación tributaria en el año dos mil dieciocho de casi quince millónes de euros con un incremento de un quince por ciento en los dos últimos años eta destacan en incrementos en el impuesto de sociedades adierazgarria dela

sobre el consejo de relaciones laborales esaten du que en el dos mil dieciocho ha habido fin del estancamiento de los salarios y que ha habido un incremento del dos por ciento sobre la economía vasca esaten du que creció un dos coma ocho por ciento en el dos mil dieciocho

de voto en las políticas de género exigiendo un cincuenta por ciento de mujeres en puestos de responsabilidad eta hori da iragartzen duena jaurlaritzak

que entre las sesenta medidas las contratas públicas reservarán un diez por ciento de plazas a parados de larga duración

gracias señora presidenta buenos días a todos bien voy a intentar no debatir precisamente porque estamos en explicación de voto y de lo que se trata es de explicar por qué hemos votado negativamente a esta toma en consideración votar en contra de esta toma en consideración no quiere decir que no estemos de acuerdo

de intentar garantizar una vida digna de reconocer el papel que la administración a través de los contratos puede hacerlo pero consideramos que a través de esta proposición de ley pues no considerábamos que se fuera a conseguir

a favor precisamente de que las cláusulas sociales puedan incluirse en los contratos públicos por qué hemos votado en contra de esta proposición que viene a ser una transposición de la norma foral de gipuzkoa y que precisamente por ser esa transposición en algunos casos bueno pues es difícil llevarla o aplicarla

hemos votado que no porque consideramos que técnicamente está está desfasada y está superada por la nueva y reciente legislación en materia de contratación pública que se aplica en todo el estado desde el nueve de marzo de dos mil dieciocho la aprobación de la directiva dos mil catorce barra veinticuatro del parlamento europeo y del consejo del veintiséis de febrero de dos mil catorce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

en cada expediente de contratación también añadió nuevos criterios de valoración incluyendo las cláusulas sociales y el cálculo del coste del ciclo de vida que corregían el anterior criterio preferente del precio más bajo u oferta económicamente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

preceptiva y transversal en todos los procesos de contratación pública concretamente en su artículo

que estaba superada la variedad de tipología de cláusulas sociales laborales medioambientales éticas de género y lingüísticas

diputaciones y otras administraciones habían incluido en sus diversas normativas e instrumentos de contratación a la espera del desarrollo reglamentario de esta ley la obligación de introducir este tipo de cláusulas en los pliegos de contratación

para decidir su inclusión en cada contrato como criterio de adjudicación como criterio de preferencia en casos de empate o como condición especial de ejecución eso significa que se pueden introducir las cláusulas en las

del proceso de contratación siempre que se respeten eso sí como no podía ser de otra manera los principios de transparencia

y no discriminación de las empresas licitadoras por lo tanto las posibilidades de inserción en los contratos públicos de este tipo de cláusulas son infinitas corresponderá

o entidad integrada en el sector público vasco mediante el correspondiente programa de gobierno

cuáles son los objetivos que se quieren cumplir en cada proceso de contratación y en virtud de eso cuáles son las cláusulas que se incluyen así podrán preverse o introducirse cláusulas de contratación socialmente responsables en los siguientes apartados de un pliego

en la selección de las empresas licitadoras mediante reserva social del contrato reconociendo expresamente el acceso a la contratación a las pequeñas y medianas empresas empresas de economía social centros especiales de empleo o centros de inserción o programas de empleo protegido también se podrán incluir cláusulas sociales como criterios de adjudicación o en el cumplimiento en casos

en condiciones especiales de ejecución de contrato queremos como observa también el gobierno en la manifestación de su criterio que a través de esta proposición se pretende regular a través de una normativa contractual materias que no le competen y que competen al orden o a la legislación laboral salarial o que son propias de los

ajustado que se incluyan por otra parte la regulación

la relativa a la denominada comisión técnica de verificación y evaluación del cumplimiento de las cláusulas de carácter social contiene

que solo está pensada para la administración general de la comunidad autónoma del país vasco

la diputación foral o ayuntamientos de determinados tamaños pero en ayuntamientos pequeños como en araba que existen muchos pues no tienen esos dos funcionarios que exigen

no sería aplicable la proposición que hoy se ha traído aquí se inspira como hemos dicho antes

de la diputación foral por lo tanto no consideramos que sea aplicable aquí

de funcionamiento de la mesa de contratación viene a confundir lo que es una mesa de contratación que se constituye para la tramitación de varios procedimientos con lo que sería una especie

desfasada obsoleta técnicamente muy mejorable que no aporta nada salvo inseguridad jurídica y confusión y que su aplicación sí que sería estéril para conseguir el objetivo
que se pretende muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

intervengo con el ánimo revuelto y el alma dolida en este turno

explicaré exclusivamente por qué hemos votado en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley que presenta el grupo parlamentario de eh bildu porque pese a que en su justificación de la iniciativa usted propugna la oportunidad que significa la introducción de cláusulas sociales en el desarrollo de la contratación pública para un mejor cumplimiento de los intereses sociales y la protección del bienestar de personas o cuidado del medio ambiente cuando usted desarrolla las mismas reincide en cuestiones

en tanto que el objetivo de las mismas es garantizar la calidad del empleo a través del obligado respeto a los derechos laborales de los trabajadores que como todos conocemos o ya deberíamos

no el que nos apetezca a nosotros evitar la precariedad exigiendo el cumplimiento de estas condiciones en toda la cadena de subcontratación porque creemos que esta es también la única forma de garantizar la calidad de los servicios

este parlamento con los votos de los socialistas aprobó la ley tres barra dos mil dieciséis para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública por lo que ya desde el dos mil dieciséis en los pliegos de contratación

las medidas de promoción de la igualdad de género la integración de inmigrantes o la contratación de personas con discapacidad entre otras a esto

desfavorable la entrada en vigor hace menos de un año de la ley nueve barra dos mil diecisiete de contratos del sector público ha supuesto

por el de la mejor relación calidad precio por lo que la evaluación de las ofertas se deberá realizar atendiendo no solamente a criterios económicos sino también cualitativos entre estos criterios cualitativos los órganos de contratación podrán elegir

que introducir alguno de ellos por lo que la ley estatal ya ha venido a reforzar la importancia de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública

como condiciones especiales de ejecución que es lo que se realizaba hasta ahora sino también como criterios de adjudicación eso sí siempre con el límite de que las mismas no sean discriminatorias y sean compatibles con el derecho de la unión

propone puesto que ya podemos aquí actuar de esa manera y eso es lo que precisamente eh bildu no respeta en su proposición de ley y de la que nos advierte el criterio negativo emitido por el gobierno es una clara advertencia de ilegalidad y no es una excusa es una advertencia clara de ilegalidad

así como con la jurisprudencia que ya tiene dictada el tribunal de justicia de la unión europea

reinciden desde eh bildu en sustituir a los agentes sociales en quienes reside la capacidad de negociación colectiva y por tanto de aprobación del convenio colectivo sectorial de aplicación al sector en el que se coordine la contratación pública pretendiendo como siempre

de ley y lo hace con reincidencia pero también con alevosía porque pretende aquí fijar nuevamente un convenio colectivo específico

fue declarada ilegal por la sentencia mencionada del tribunal supremo cuando se pretendió en gipuzkoa

en este parlamento pero es que resulta curioso porque lo decíamos la semana pasada y lo vamos a repetir esta en nafarroa se acaba de aprobar una ley foral de contratos públicos con cláusulas sociales geroa bai

aplaudida en aquel momento por comisiones ela y lab destacaban que a través de la ley que se acababa de aprobar se había introducido un cambio de paradigma que en detrimento de la oferta económica más ventajosa introducía un nuevo modelo de contratación basado

con un carácter transversal y preceptivo yo he revisado esta ley que no tiene ni un año de vida

a lo que eh bildu nos propone ni convenio de referencia ni salarios mínimos ni comisiones de verificación será que no tienen derechos los trabajadores navarros como se pretende que tengan

al revés en su puesta de largos se destacaba que esta era una ley que como novedad en materia laboral iba dirigida a garantizar

al convenio sectorial de aplicación estableciendo que serían las retribuciones marcadas en este convenio sectorial de ámbito más cercano vigente o en ultraactividad las mínimas a abordar se libraron muy mucho de escribir otras cosas y esto señorías de eh bildu no es un olvido y lo saben y es simplemente más

jugar con los tribunales jugar con los titulares

generar falsas esperanzas y frustrar a aquellos a quienes consiguen engatusar por todo eso ha habido un voto negativo y rotundo

hemos votado a favor vamos a explicar las razones de nuestro voto en primer lugar y a pesar de que

en relación con la contratación pública es relativamente reciente hemos defendido desde nuestra llegada a este parlamento en esta legislatura que creemos que hay margen

para la administración pública lo hagan en condiciones dignas en las mejores condiciones posibles y también para garantizar el respeto al medioambiente por aquellas empresas y para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres la realidad en nuestra opinión es que

laborales y denuncias sindicales al respecto de empresas que trabajan para la administración pública en nuestra comunidad empresas cuyas trabajadoras y trabajadores no solo no lo hacen en las mejores condiciones posibles sino que en no pocas ocasiones lo hacen en condiciones malas e incluso de precariedad

en multitud de ocasiones en la propia comisión de trabajo por ello desde nuestro grupo no estábamos dispuestos a cerrar el paso a una proposición de ley en cuyo trámite posterior podíamos trabajar para mejorar las herramientas legales con las que mejorar las condiciones de trabajo de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de empresas que contratan con la administración

muchas y muchos trabajadores en segundo lugar no hemos

para modificar esta posición previa no compartimos el criterio del gobierno respecto a la incompatibilidad con las directivas europeas la ley estatal y la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea un criterio que ni siquiera explica qué preceptos legales o jurisprudenciales

se incumplen y no compartimos el criterio del gobierno sobre la imposibilidad de incorporar cláusulas en materia laboral y salarial en la normativa contractual

para oponerse a mejorar las condiciones laborales y salariales de trabajadoras y trabajadores bajo ámbitos de su responsabilidad condiciones que como decía a día de hoy

inaceptables añadiríamos no obstante que el criterio del gobierno no hubiera sido determinante en cualquier caso a la hora de que nuestro grupo fijara la posición tanto en cuanto creemos que la discusión sobre el encaje jurídico de las propuestas legislativas puede ser solventado durante el proceso de tramitación de la ley con las comparecencias

necesarios pensamos que si los grupos tenemos voluntad política de aprobar mejoras sociales por ley de contratos públicos la toma en consideración de la proposición

para ello con informes jurídicos que posibilitasen ajustar los contenidos al máximo del objetivo y voluntad política dentro de lo legalmente posible y en tercer y último lugar hemos votado a favor de la toma en consideración porque el contenido de esta proposición

podemos también en otra proposición de ley que registramos hace algún tiempo en este parlamento y por lo tanto pretendemos ser coherentes en la defensa de nuestras posiciones políticas

para finalizar quisiéramos manifestar que también en nuestra reflexión sobre el sentido del voto hemos tenido en cuenta que algunas de las cuestiones más polémicas de la proposición

que se ha explicado hoy son cuestiones sobre las que hemos trabajado y que creemos que tienen fórmulas posibles para poder ser llevadas a las prácticas

que está en vigor se ha hecho referencia anteriormente a la misma estas son las razones por las que desde nuestro grupo hemos votado a favor para que se iniciase el trámite y que desgraciadamente ha sido rechazado por una mayoría conservadora

por lo menos cuatro veces de forma directa recientemente y otras tantas de forma indirecta la última el jueves pasado

iniciativa que decayó también hace cinco meses el veinticinco de octubre y en la tramitación de la ley tres barra dos mil dieciséis de siete de abril de inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública

iniciativa legislativa popular ley que fue aprobada por este parlamento con seguridad jurídica y en el escaso margen que el ordenamiento jurídico vigente le deja a euskadi

en materia de contratación pública y derecho laboral por lo tanto me remito íntegramente a la posición mantenida por mí misma y por mi grupo en dichos debates

ezer berririk ekartzen posiblea edo legala izan daitekeena el gobierno vasco ha emitido su criterio desfavorable como entendemos que no puede ser de otra forma basado en motivos que este grupo parlamentario comparte y principalmente

relacionados con la seguridad jurídica y por otro lado que no excusas sino legalidad realismo y por otro lado

en materias como brecha salarial igualdad derechos lingüísticos medioambiente un montón de materias que están ya recogidas

en otras normas ya en vigor por lo tanto en esos dos bloques entendemos

acuerdos en lo relativo a la seguridad jurídica se ven se aprecian serios visos de ilegalidad por un lado como hemos dicho muchísimas veces no se puede establecer un salario mínimo a través de la contratación pública tampoco se puede establecer imponer el convenio colectivo a través de la misma porque es la legislación laboral la que debe establecerlo

a día de hoy sigue perteneciendo al estado por otro lado en lo relativo a la subcontratación también vemos serias dudas de legalidad en algunos aspectos recogidos en la iniciativa que hoy se ha presentado y por otro lado en lo que no tiene esas dudas entendemos que también está superado por normativa existente y no precisamente nueva y por otro lado sigue recogiendo disposiciones que ya han sido declaradas incluso nulas

por la jurisdicción ordinaria y en concreto luego sentencias del tribunal superior de justicia

creemos que los salarios deben ajustarse a la realidad socioeconómica de cada territorio pero no es competencia de este parlamento fijar un salario mínimo

no puede interferir en la negociación colectiva es a los sindicatos y patronales quienes corresponden fijar

y por otro lado no es competente porque es materia de legislación laboral que este parlamento

euskadi no tiene esa competencia otra cuestión sería avanzar en cuestiones que alteren el reparto

esta cuestión excede totalmente de esta proposición de ley y

en el criterio del gobierno por la ley nueve barra dos mil diecisiete

y por otro lado por acuerdos importantes adoptados en el consejo de gobierno

igual que la norma foral de gipuzkoa del año dos mil trece de

de obras para el sector público de dicho territorio tan idéntica que sigue recogiendo las disposiciones que ya han sido anuladas por el tribunal superior de justicia en la sentencia

seiscientos diecisiete barra dos mil catorce y ratificado por el tribunal supremo

además sentencias y en la parte que no anula dice

lo que determine la legislación laboral por lo tanto en la parte que no está anulada sería interpretativo y habría que seguir derivándose a lo que diga la legislación laboral esta iniciativa sigue recogiendo referencias a normativa derogada y por otro lado

en la otra parte son cuestiones totalmente superadas por lo tanto hemos votado

es proactivo y ejemplar dentro del marco legal vigente con seguridad jurídica

y en seguir mejorando la calidad del empleo en concreto y la calidad de la ciudadanía vasca en general

bueno esta es una moción que presentamos consecuencia de interpelación y en la que queríamos buscar puntos de encuentro los hemos conseguido y

extenso en mi explicación y con brevedad el debate lo hemos tenido recientemente el debate sobre la situación política la situación humanitaria de venezuela con la aprobación de aquella enmienda de transacción a la proposición no de ley sobre esa situación política y humanitaria en este país y también hemos podido hablar

sintonía sobre seguir trabajando por la población vasca en venezuela por la población vasca venezolana o por los venezolanos de origen vasco por tantos vínculos

que tenemos en común y en ese sentido a partir de eso hemos visto y seguimos viendo cómo cada día se agravan

en las noticias vemos la situación cada día peor en ese país progresivamente el deterioro el deterioro

alrededor de él el deterioro de las condiciones de vida de la población en venezuela

vive peor vive en peores condiciones y también todos los días

llamadas de ayuda desde ese país al mundo para su liberación y salir sobre todo de la precariedad y de la pobreza y de las ínfimas condiciones

de vida en ese país entendemos una cuestión como

ayudas pero hay que seguir está claro profundizando en esa articulación y es bueno además

vasco venezolanos las personas de origen vasca en venezuela nos miren que nos vean preocupados por su situación

que estamos pendientes y que podemos hacer cosas y que las queremos hacer ese es el elemento fundamental que a una de las consideraciones de la enmienda de transacción y después a la interpelación y ahora a esta moción con el acuerdo que hemos firmado en estos días también además de la constatación del agravamiento de la situación en venezuela estamos viendo también que otras instituciones se siguen preocupando hace poco

el parlamento europeo volvió a aprobar otra resolución es llamativo porque en este mismo año ya lleva aprobadas dos resoluciones el parlamento europeo y en esas resoluciones se decía en sus considerandos cuestiones

con la situación la consecuencia de una crisis política está atravesando una crisis pluridimensional sin precedentes que afecta a un número cada vez mayor de personas el alto comisionado de naciones unidas para los refugiados desde dos mil catorce

que si bien el éxodo de la poblacion de venezuela ha sido provocado principalmente por una crisis humanitaria la huida de muchos venezolanos también se debe a una represión gubernamental que ha llevado miles de detenciones arbitrarias enjuiciamiento de civiles

y también considera que los venezolanos se enfrentan a un desabastecimiento de medicamentos productos sanitarios alimentarios lo que socava

los índices cada vez más elevados de mortalidad materno infantil un aumento espectacular de enfermedades contagiosas y unos niveles de inseguridad ciudadana y

infantil sigue considerando que la negativa del régimen a reconocer la situación de emergencia humanitaria provocó una escalada de la tensión en estos meses

en ese sentido para certificar el deterioro de la situación es decir incluso habla esa resolución del propio apagón el apagón los apagones

eso lleva a una serie de consecuencias también que nosotros también las tenemos que hacer nuestras porque el parlamento europeo también ha hecho una serie de manifestaciones

profunda preocupación por el empeoramiento de la situación en venezuela y solidaridad lógicamente pero a renglón seguido a poner deberes y a que la unión europea ya comprometa fondos en este caso

ayuda al desarrollo a lo largo del pasado año pero eso tiene que seguir

que sentir llamados a que prosigan sus esfuerzos durante algún tiempo y en el marco de estas declaraciones de las nuestras propias y de las instancias tan importantes como el parlamento europeo

una moción consecuencia de la interpelación que tuvimos en el pleno de control anterior y en el que

con el lehendakari de esta situación y certificamos desde luego la

haciendo esfuerzos desde aquí nosotros presentamos una moción donde pedíamos aplicación de las políticas de cooperación derechos humanos acción exterior y colectividades vascas y tras los pronunciamientos de esta cámara

en relación con las personas la situación de venezuela y las personas vascas venezolanas se elaborase un plan integral de acción que recoja medidas necesarias para propiciar y promover ayudas económicas y la posibilidad de retornos hablábamos de eso

muy satisfactorio para seguir avanzando vuelvo a decir es reflejo y es necesario para que nos vean desde allí que seguimos en esta cámara en este parlamento vasco

llegar a un acuerdo como al que hemos llegado que paso a exponer hemos firmado una enmienda de transacción

aguirre su disposición y su talante desde luego facilitar el acuerdo el parlamento vasco

su último pronunciamiento a favor de la acción humanitaria con la población de venezuela y en concreto con las personas vasco venezolanas insta al gobierno vasco a que en aplicación de sus políticas de cooperación

desarrollando efectivamente eso es lógico y reforzando

y promover esa ayuda humanitaria desde una perspectiva de globalidad incluyendo medidas de retorno

hay cosas que se pueden hacer enmarcamos alguien verá que nos preocupamos incluso de la posibilidad del retorno si fuese necesario y

y eso es una buena aportación que en tanto se mantenga la situación

remita anualmente a este parlamento el balance de solicitudes de ayudas humanitarias recibidas así como las medidas de respuesta puestas en marcha

buena que tengamos que tener eso que responderá además a la posibilidad de cómo se arbitran esas ayudas a la población vasco venezolana y a quien nos lo pida bueno y a la población venezolana en su caso y en ese sentido

satisfechos del trabajo en relación con poner ese grano de arena por ser en esta cámara altavoz o por lo menos reflejo

desde nuestro gobierno y en este caso desde nuestro parlamento y lógicamente pues agradezco de nuevo a los portavoces del partido nacionalista vasco y partido socialista
su sensibilidad muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

ayuda humanitaria toca hablar de cooperación de solidaridad algo que hicimos hace unas semanas que lo hicimos de una forma más extensa que lo hicimos

para no repetir la argumentación es mejor centrarse en lo que refleja la voluntad de esta iniciativa que es como digo hablar de ayuda humanitaria de cooperación y de solidaridad venezuela sigue siendo noticia por todas las calamidades que está pasando

por la falta de medicamentos por la falta de atención a la ciudadanía en las necesidades más básicas por los apagones por la inseguridad por la criminalidad sigue siendo noticia por el exilio por la salida del país de muchos ciudadanos y ciudadanas que no encuentran

allí y yo me atrevo a afirmar que estamos ante un estado que puede considerarse como estado fallido un estado que ha fracasado en lo político en lo económico en lo social

vive una situación imposible para proteger y para atender a la ciudadanía en esas necesidades básicas como ya se ha citado

además aproximadamente el ochenta y siete por ciento de la población en estos momentos vive en la pobreza de ellos un sesenta y uno por ciento

todos los días muriendo personas porque no hay las condiciones suficientes para darles quimioterapia a quienes sufren el cáncer o para atender dolencias

delicadas crónicas por la falta de suministro de luz o por la falta de suministro de medicamentos

de ese país porque no pueden hacer su función estamos por lo tanto ante cifras que son absolutamente alarmantes en todos los campos que podamos

de criminalidad en venezuela es

en toda latinoamérica de los trescientos treinta y cinco municipios que tiene venezuela aproximadamente el ochenta y cinco por ciento están en alerta por epidemias se han multiplicado las enfermedades de carácter infeccioso o vírico bueno la situación es de absoluta emergencia y además una ocupación de un gobierno que está impidiendo la ayuda humanitaria de la comunidad internacional en ese sentido

ser un país solidario solidario con todas las personas que sufren este tipo de situaciones con dedicar recursos propios

de esa manera de esa forma humanitaria para poder llevar medicamentos para poder llevar alimentos para poder llevar la asistencia que se requiere hay programas

pero en concreto con venezuela además como se ha reflejado en la iniciativa y también en la enmienda

transaccional que finalmente se ha hecho hay una ciudadanía

que también se viene atendiendo y ayudando desde hace muchísimos años y que le viene muy bien cualquier signo cualquier rasgo

se plantea además que esta sea una atención de carácter integral no solamente atendiendo en origen sino también posibilitando retornos pudiendo

para que estas personas vayan encontrando un futuro mejor mientras se va resolviendo la situación política del país y mientras se genera esa necesaria transición política por la que este parlamento ya ha tomado también posición para que se recomponga la democracia en el país para que la representación de la ciudadanía sea una representación legitimada por las urnas

atiende a esas necesidades básicas fundamentales de los ciudadanos estamos hablando de un país que hace muy poco tiempo era un país rico hoy es un país

con una incapacidad total de gestionarse con una incapacidad total de atender a los requerimientos de momento

que se ha aislado de la comunidad internacional que ha hecho todo lo que ha estado en su mano incluido la utilización del ejército para impedir que esa ayuda humanitaria

bueno y en esta situación tan caótica obviamente no podemos quedar cruzados de brazos no podemos mirar para otro lado

lo hizo también recientemente es justamente lo que está haciendo con sus programas el gobierno vasco y esta es una iniciativa con una enmienda transaccional que lo que quiere es elevar el tono y reforzar

tan necesaria que en otras ocasiones la hemos recibido nosotros como ciudadanos también del mundo y que ahora necesitan recibirlo ellos también como ciudadanos del mundo por lo tanto

tratada en estos términos creo que debiera ser respetada de una u otra forma por el conjunto de esta cámara porque la ayuda humanitaria

y no debe tener ningún comportamiento que ideológicamente trate de impedirlo como en más de una ocasión se ha hecho este es el sentido

como grupo parlamentario y espero que sea también el sentido del conjunto de esta cámara gracias eskerrik asko prieto jauna

le contestó el lehendakari hace dos semanas en esta misma cámara y

del gobierno vasco para ayudar a la población venezolana en general especialmente

especialmente en valencia carabobo estado de carabobo y también en caracas pero también para

y que necesitan ayuda de todo tipo para vivir aquí en euskadi por lo tanto yo distinguiría entre estas dos patas de la ayuda vasca del gobierno vasco hacia la coletilla vasca y hacia la de venezuela pero también y hacia la población venezolana en general eta

laguntza eta babesa ematea y yo creo que esta

nos da el paraguas legal para ayudar en la medida de nuestras posibilidades tanto financieras como legales las colectividades vascas del exterior y la gente que ha vuelto pero también nos da un marco para poder ayudar otras

y más allá de lo que ya comentaba el artículo once de la ley también prevé una serie de prestaciones en favor de los miembros de las colectividades vascas que tienen condición política vasca es decir que se corresponde al artículo siete punto dos del estatuto de gernika

prestaciones sanitario asistenciales y de asistencia social

de acreditar un periodo de residencia previa en euskadi también prevé convocatorias de adjudicación

en la que no se exigirá la acreditación de ningún periodo de residencia previa como requisito para la solicitud

cumplan con el resto de las condiciones de la convocatoria y cuando se trate de atender

la convocatoria de adjudicación de viviendas sociales podrá establecer la condición de retornado como un mérito adicional a efectos de baremación y por fin también

adoptarse para facilitar el viaje de regreso a euskadi con el fin de fijar aquí su residencia por lo tanto este paraguas legal de hace ya veinticinco años nos permite llegar o contestar

residente como la de aquí y es cierto como decía el lehendakari que la gran parte de la comunidad vasca de venezuela es fruto

y que la enorme mayoría también posee únicamente la nacionalidad venezolana y por lo tanto no se puede acoger a lo que prevé el artículo

lo que han hecho otras comunidades autónomas como la gallega o la asturiana ya que las condiciones no son iguales por otra parte las ayudas

ayudas de extrema necesidad esto ya lo prevé la ley en uno de sus artículos pero la primera vez que se puso en marcha fue para responder a la situación delicada que padecía la comunidad vasco

en el año dos mil tres después del corralito bueno en el caso

en el año dos mil dieciocho y se atendieron a ciento nueve familias de cinco países diferentes pero en el caso de venezuela se atendieron al cien por ciento de las demandas

que está abierta hasta el veinticinco de abril pues hace especial hincapié

en esta convocatoria y ver paliada en cierta medida la situación de necesidad que padecen las dos euskal etxeak que hoy en día

y la de caracas han recibido en el periodo dos mil quince dos mil dieciocho

que posiciona a estas personas de cara al retornado de cara a los servicios públicos

en las mismas condiciones que cualquier persona que esté viviendo aquí cualquier ciudadano o ciudadana

por otra parte ha habido una comunicación sistemática entre la secretaría general de acción exterior pero también

con el colectivo de tierra de gracia que reagrupa no solamente a

a venezolanos que viven aquí en euskadi y que puntualmente

y de las necesidades que tiene la colectividad venezolana o vasco venezolana aquí en euskadi

contactos con diferentes instituciones internacionales por ejemplo con la cruz roja internacional pero también con la organización panamericana de la salud también con colectividades religiosas como también con los jesuitas el padre luis ugalde que ha sido un hombre que ha dedicado toda su vida a venezuela

las necesidades de la población de venezuela y hace poco porque usted también lo recordaba venezuela no permitía llegar o no permitía la entrada de ayuda internacional pues hace poco la cruz roja

la cruz roja internacional aseguró que iba a entrar en venezuela y sin aceptar interferencias políticas iba a

especialmente en el tema médico por otra parte ayudas

de origen vasco o no vasco que llegan a euskadi bueno pues desde el gobierno se han ayudado se han atendido a un total de novecientos sesenta y cinco personas

de ellas cuatrocientos treinta y siete han sido beneficiarias de ayudas que comprenden alojamiento

asesoría legal apoyo psicológico junto al acceso

educación etcétera que ofrecen las instituciones vascas por otra parte se ha concedido la rgi a doscientos sesenta y siete unidades convivenciales

social se estiman que seiscientos cuarenta personas de origen venezolano se han

porque el dato de nacionalidad no se requiere a la hora de prestar el servicio

y convivencia intercultural y esto también ha permitido ayudar

ia lau astetan ekartzeko pleno honetara además me alegro de poder expresar

las presiones desde el público porque en la defensa de la proposición no de ley que usted presentaba

económica y en eso estamos de acuerdo que la economía no ha ido bien es un tema evidente y estamos de acuerdo pero bueno la iniciativa que ustedes traen en estos momentos viene derivada de la iniciativa

en este punto del debate porque esta iniciativa viene de una iniciativa que buscó apoyar a un señor

le reconoció señor al que por cierto respaldaba también el señor pedro sánchez que le dio un ultimátum a maduro de ocho días para convocar elecciones y creo que le salió un poco mal el cálculo porque ya casi llevan cien y ni maduro ha convocado elecciones aunque ha propuesto elecciones legislativas y guaidó tampoco porque no tiene legitimidad ninguna para convocarlas esa es la política internacional de españa en estos momentos un momento en el que

las sanciones económicas que ha sufrido venezuela ascienden según el celag a doscientos cuarenta y cinco mil millónes de dólares y vuelvo a decir lo mismo estas sanciones no afectan al gobierno de venezuela

pueda vivir en libertad y millónes de dólares de fondos

señor barrio y por qué si queremos ayudar a venezuela y el banco europeo que tiene bloqueados una compra de mil seiscientos cincuenta millónes de dólares de medicamentos venezolanos y por qué si queremos ayudar a venezuela

se niega a enviar un cargamento de compra de medicinas en qatar por qué el gobierno de españa no ha respondido esa orden que le dio a esa solicitud de información para esa orden que le dio a iberia por qué porque estamos jugando a otra cosa

es que en mitad del sufrimiento del pueblo de venezuela hay un golpe de estado permanente para derrocar a un

en virtud de los acuerdos que tenía anteriormente con la oposición y controlados a nivel internacional

permanente y no será gratis eso que dice guaidó que si se marcha maduro el día siguiente funciona el agua funciona la luz funciona todo

que se permite jugar con el sufrimiento del pueblo de venezuela me parece tremendamente irresponsable tremendamente irresponsable nik esango nuke

y claro que hace falta ayuda y quizás esta que vais a aprobar en este momento llegue habrá que verlo pero la realmente necesaria y la realmente importante

haya elecciones legislativas en el año dos mil diecinueve y en las que toda la oposición participe y que gane quien el pueblo venezolano diga pero que haya diálogo que haya un marco para el acuerdo para el diálogo y para la paz ayuda humanitaria hay señor aguirre se le ha olvidado complementar la información que ha dado porque hay muchos países y me dirán rusia china cuba no no

pero es que fuera de todo eso digo por la respuesta la cruz roja internacional tiene un plan y la cruz roja internacional

todas esas agencias están trabajando ahora mismo allí desde hace muchos años mucho antes de la llegada del chavismo y ahora también continúan allí

organización panamericana de la salud dicen que sus programas ya han ayudado

personas y hará falta muchísimo más seguro y tendrá que ser en ese marco de respeto a la legalidad y al trabajo por la paz y el diálogo

alguno de ustedes tres dijo que un camión fue quemado por el gobierno de venezuela un camión de ayuda humanitaria que fue quemado en la frontera no elkarrekin podemos y no iñigo martínez zatón sino la cnn ha desmontado eso que fueron guarimberos que estaban

ese camión de ayuda humanitaria desde este país se ha responsabilizado a esa gente de quemar la ayuda humanitaria no hagamos fuego cuando la ayuda humanitaria está entrando todos los días

la de países amigos de ese gobierno y las de la cruz roja la de la onu la de la organización panamericana de la salud y la de

todos los días el concierto por cierto ese de cúcuta que recaudó casi treinta veces menos de lo que

ayuda humanitaria que pretendían entrar

no voy a perder mucho más tiempo en este debate que creo que es falso señor barrio porque usted es muy exigente con el gobierno de venezuela

llevamos no sé un año casi con una declaración institucional que condena la represión del pueblo mapuche no sé meses y nos dice que no está seguro de la responsabilidad del gobierno cuando hay imágenes y hay testimonios

a población mapuche o no dice nada ni usted ni su partido

sobre que un diputado electo en brasil después de la elección de bolsonaro haya tenido que salir huyendo porque no tenía garantías de protección un diputado de izquierdas un diputado homosexual que estaba recibiendo

que va cada día más en argentina de macri pero como macri es amigo de ustedes pues tampoco dicen nada

o de orbán que por lo menos hasta el día de hoy es miembro del partido popular europeo

por mucho que hayan iniciado un procedimiento en el partido popular europeo todavía lo es o no dicen nada

o no dicen nada ninguno de los tres partidos políticos de que haya

en yemen no dicen nada de eso y firmamos acuerdos comerciales nos hacemos fotos con empresas de arabia saudí que lo que son son sátrapas que están

genocida del estado de arabia saudí o no dicen nada del genocidio

del estado de israel hacia el pueblo palestino creo que además tenemos alguna noticia esta semana sobre ello

con israel señor barrio firmamos declaraciones institucionales a favor de los refugiados en este parlamento vasco pero de mientras mientras ustedes gobernaban en el gobierno de españa esas cárceles ilegales para pobres que son los cie se mantenían abiertas

menos doble rasero atendamos a todas las personas por igual a las personas que piden ayuda desde venezuela también

también lo digo por las posibles respuestas que puedan hacer

en venezuela que lo haga si cumple los requisitos

de la iniciativa pero me parece curioso que el partido nacionalista vasco y partido socialista firmen esta iniciativa cuando están amparando un recorte de cinco millónes de euros

y a programas un recorte que además incrementa ese incumplimiento de una ley

con ese no gasto de cuatrocientos cincuenta y tres millónes de euros que

no somos capaces de llegar a ese cero coma siete por ciento y además me sorprende que el partido nacionalista vasco firme una declaración

a la comunidad vasca en el exterior que necesitará me imagino del apoyo de las delegaciones del exterior de euskadi para poder hacerse como así se hace desde la dirección de colectividades y también desde las delegaciones que tenemos en estos países con el partido
que quiere eliminar esas delegaciones amaitzen joan mesedez me parece una fórmula
de hacer acción exterior de país como le llaman ustedes laburbilduz gure konpromisoa eta elkartasuna venezuelarekin

konplizitatea lortu baititu una parte del éxito no es solo mérito suyo

gracias presidenta bien para ser breve yo creo que me sobrevalora

la verdad que la teoría política o teoría vamos social que ha puesto sobre la mesa de los marcos estaba muy interesante y supongo que servirá en algunas cuestiones

establecer una estrategia tan sencilla es decir yo hice un esfuerzo además cuando después

de la interpelación con el lehendakari hice un esfuerzo en hacer una iniciativa absolutamente despojada

en la población vasco venezolana y buscando eso buscando ese apoyo además es que

me parece que lo he hecho bien porque hemos llegado a ese acuerdo y se va aprobar ese acuerdo y precisamente la población

sigue desarrollando reforzando acuerdos en su favor si lo necesita y como se está claro que lo necesitan hemos hecho algo

globos sonda hablar de globos sonda en relación con estas cuestiones

si usted quiere denominar a este tipo de acuerdos o este tipo de actitudes globos sonda ustedes lo han querido pinchar y no es imposible que lo pinchen porque

que el señor martínez zatón en relación con tratar de pinchar este globo o sea es imposible es decir

todo lo que se mueve es decir usted viene a la tribuna y le valen todos los argumentos

pero luego todos los demás luego nuestras iniciativas en otros temas nuestros debates estamos hablando de lo que estamos hablando en este momento no sé hay que centrarse un poco no se lo digo políticamente digo en el discurso señor martínez yo

hay que ayudar pero voy a votar en contra de esta iniciativa pero esta iniciativa es de ayuda y de apoyo fíjese usted léasela por favor

las medidas y la posibilidad del retorno a parte de las que ya he explicado excelentemente el señor aguirre y pedirle al gobierno una información

ni de maduro ni de trump o sea estamos hablando de lo que estamos hablando de lo que quieren que hablemos de verdad los que lo están pasando mal y los que nos miran a nosotros en este momento es decir el objetivo es decía que no sabe cuál es el objetivo de esta iniciativa que va a votar en contra el objetivo de esta iniciativa es dar apoyo a los vascos venezolanos de venezuela

mal a los que nos miran y nos piden ayuda y nosotros estamos dispuesto a dársela

y supongo que estarán muy desconcertados muchas de esas personas cuando oigan sus intervenciones sus intervenciones apartándose de esa obligación nuestra porque ya no es es decir que yo

es decir el gobierno no suele traer iniciativas generalmente bueno pues espera a que la oposición las traiga y yo las he puesto sobre la mesa no la iba a traer usted ni la señora etxebarrieta la he traído yo la traje yo al debate

y es una incoherencia para usted no sería una incoherencia votar una enmienda de transacción política es una incoherencia no votar una moción humanitaria y de ayuda

no me diga y usted me habla de otras cuestiones de otros países de otras realidades

todos los días no sale a millónes huyendo de la pobreza y de la extrema pobreza ahí no se dan esas condiciones

en el momento que pueda haberlas las criticaremos y hay otras cuestiones que podemos tener dudas tal y como los plantean los otros yo no voy

sencillamente necesito elementos de juicio yo no soy

que tipo de tribunales en ese sentido hay que tener muchos más elementos de juicio

como las que ha planteado usted y desde luego exigiremos investigaciones y esclarecimiento de hechos

estados de derecho perfectamente democráticos con constituciones vigentes

y democráticos y con elecciones yo creo que no sirve de nada o sea que no distraiga usted la atención este tema yo creo que

yo creo que ese es el asunto fundamental se le está yendo de las manos señor martínez muchas gracias

expresar y practicar la ayuda humanitaria la verdad es que necesita de muy poca explicación su mismo nombre indica lo que quiere decir es ayuda

sí que necesita de mucha más explicación negarla necesita necesita mucho envoltorio necesita darle muchas vueltas necesita mezclar muchas cosas

necesita comparar con otros países necesita coger cualquier incidente para anteponerlo a esa ayuda y eso es lo que ha dicho la señora etxebarrieta y lo que ha hecho el señor martínez

escaparse de esa ayuda humanitaria

de utilizar mediante las palabras una variante de un no a la ayuda humanitaria esto es lo que ustedes van a votar hoy en esta cámara

que vamos a votar ayuda humanitaria para las personas de venezuela y ustedes van a votar no a esa ayuda humanitaria

es alimentos es medicamentos ayuda humanitaria es movilidad es tener

retornos ayuda humanitaria es eso ayuda humanitaria es cooperación y solidaridad ayuda humanitaria no es tomar posición

un aspecto ideológico o por un aspecto programático o por un modelo de país o por un modelo de gobierno ayuda humanitaria es llevar aquellas necesidades básicas que un estado no es capaz de suministrar a sus ciudadanos mediante esa cooperación y esa solidaridad internacional

hacer aquí obviamente a eso que ustedes niegan ustedes están en contra de esa ayuda humanitaria como les parece

el plantear no a la ayuda humanitaria necesitan acudir a libros a escritores a países a personajes a situaciones

el fundamento la sustancia de lo que aquí se plantea si nosotros hubiéramos querido hacer un planteamiento político de confrontación

haber relacionado a ese planteamiento político la ayuda humanitaria

iniciativa y con una enmienda transaccional que habla solo de ayuda humanitaria

en otros términos políticos como se produjo hace unas semanas efectivamente ahí había

que se contrastaron aquí pero hoy la iniciativa y la enmienda transaccional es blanca es clara es limpia es ayuda humanitaria ayuda humanitaria que tres grupos políticos de esta cámara

que se practique con los ciudadanos venezolanos y con aquellos más específicamente que tienen un origen vasco y eso es lo que dos grupos políticos de esta cámara quieren negar por otro tipo de consideraciones

ni con la alimentación ni tienen que ver con la salud ni tienen que ver con el empleo

nada de esas necesidades básicas que sufren las personas que un determinado modelo de gobernanza les ha llevado a la más absoluta de las miserias ustedes parecen querer

de que en venezuela no pasa nada de que en venezuela no hay problemas de carácter humanitario y por eso se permiten el lujo

lujo de decir no a la ayuda humanitaria en las actas del parlamento quedará su negativa a la ayuda humanitaria

eta ez dira konpondu venezuela tiene recursos suficientes más que suficientes

los que tiene desde hace pocos años como los estructurales y no se ha hecho nada pero yo no voy a entrar en ese debate que es otro ese es el debate que tuvimos hace tres semanas nik

en el debate que tuvimos sobre la anterior iniciativa de venezuela creo que fue la señora etxebarrieta la que explicó

a consensos que teníamos y que tenemos en la comisión de derechos humanos eta baita ere kanpo harremanetarako batzordean urte guztietan ez dakit noiztik

lo que no vamos a hacer es apoyar esta iniciativa que es una iniciativa de propagando política porque esta ayuda perfectamente la puede recibir la agencia vasca de cooperación puede recibir una petición

un proyecto aprobado en este año esas ayudas van a la agencia vasca de cooperación a programas a proyectos o a ayuda humanitaria en función de lo que sean

se aprueban y he dicho evidentemente ni es mi papel porque hay una normativa y una serie de planes y una serie de planteamientos

estoy seguro y confío en el trabajo de la agencia vasco de cooperación aunque sea crítico en algunas cosas nosotros no hemos dicho nada en contra de eso estamos hablando de esta iniciativa y señor

prieto voy a dormir muy tranquilo precisamente por eso porque lo que defendemos es que la política pública de cooperación y

uno en la ley de cooperación y en todos los planes de desarrollo de la agencia vasca de cooperación

a acuerdos unánimes de este parlamento y lo que seguramente la cruz roja la organización panamericana de la salud

el gobierno que gobierna en venezuela me guste más a mí les guste menos o más a ustedes han hablado con ellos y han acordado una serie de procedimientos pero no ahora hace muchos años

y eso es lo que nosotros queremos hacer seguramente el gobierno vasco no sé

de venezuela en españa que seguramente no van a tener ningún problema que si las cosas se hacen como lo está haciendo

las cosas se hagan bien pero sin ruido mediático porque su iniciativa ninguna iniciativa de ningún grupo

es ni objetiva ni no parcial y eso es así y esta iniciativa en ese sentido viene a complementar su iniciativa anterior no sé porque están secos de ideas para presentar a este parlamento han encontrado un nicho de votos en este asunto

de venezuela y señor prieto le vuelvo a decir no sé lleva usted muchos años

y le vuelvo a decir el parlamento vasco no aprueba las partidas de hecho tuvimos que aprobar esas leyes de acompañamiento porque no había presupuestos este año esto qué significa qué partida va a ser

no será mejor que la agencia vasca de cooperación haga su trabajo en base a la ley en base a sus planteamientos y a sus planes de trabajo para que si hay ong que quieren trabajar en venezuela presenten sus proyectos los presentes allí

en esa labor porque hay proyectos ideológicos muy diferentes dentro de los proyectos que se aprueban

y los requisitos administrativos eso es lo que estamos haciendo por eso tengo la conciencia

aquí en contra de ninguna ayuda humanitaria real no estamos en contra de eso estamos hablando de una iniciativa política parcial que busca lo que busca que es ruido mediático ruido político y no

lo que en realidad todos y todas nos teníamos que centrar porque si no a qué viene traer una iniciativa a pleno cuando seguramente por detrás trabajando con mucha calma con mucha cautela podríamos

políticamente ni en venezuela ni en ningún otro sitio siempre sin intereses políticos por detrás siempre sin intereses políticos por detrás

tras su último pronunciamiento en favor de una actuación humanitaria ya partiendo desde ahí si nosotras no estábamos de acuerdo

cómo íbamos a apoyar esta propuesta pero bueno sigamos siga desarrollando y reforzando las medidas necesarias

y reforzando pero sigue desarrollando y reforzando

y hemos votado muchísimas veces en contra de propuestas que tienen esta fórmula porque ya sabemos que es lo de siempre

que nos parece muy bien que la agencia vasca de cooperación tiene

que para ayuda humanitaria también hay unos procesos que hay que cumplir que todos aquellos que lo cumplan lo reciban por supuesto pero es que vamos para que volvamos a decir que siga desarrollando pues no nosotras en eso no sigo con el tema crisis humanitaria

ponerlo como si fuera una cosa neutra sabe usted muy bien

que es algo que se está utilizando y que me parece muy bien que debatamos en torno a eso pero bueno

cada uno ve lo que quiere ver y a mí me parece que cuando estamos poniendo

y analizar lo que nos parezca que es lo que hemos hecho en nuestro turno de palabra aun y todo usted decía que nosotros negábamos la mayor

porque aquí tanto el señor martínez como yo no hemos dicho en ningún momento que en venezuela se viva bien

de hecho hemos dicho lo contrario que la situación es muy grave y que necesita de diferentes organizaciones internacionales exentas

estar siendo utilizadas que es lo que estaban intentando hacer en cúcuta pero que por ejemplo cruz roja internacional pueda realizar su trabajo porque sí hay dificultad de suministros que ya lo mencionamos hace cuatro semanas en el debate que

el que luego sale usted diciendo aquí que nosotros no décimos nada es para que quede

somos y lo que venía diciendo en el primer discurso ustedes crean el marco y les da igual pero completamente e igual lo que nosotros tengamos aquí que decir

que se pide que anualmente al parlamento se le traiga un balance de solicitudes de ayudas humanitarias recibidas así como las medidas de respuesta puestas en marcha por el gobierno vasco

le vamos a votar a esto que no al conjunto que no porque

por qué tenemos que recibir anualmente algo con venezuela que nos parece y vuelvo a decirlo puede ser interesante pero hay

y que ustedes de nuevo vuelven a poner el foco solo en uno por qué aquí no aparecen el nombre de otros países si estaban intentando hacer

eskerrik asko mahaiburu andrea hoy traemos a esta cámara una moción

y que se encuentran en una situación de precariedad para ello hay que explicar que las políticas de subcontratación y externalización son una plaga que se ha extendido por toda la estructura económica y productiva así como también en las administraciones públicas

público vasco el objetivo muchas veces no es realizar de forma más eficiente los servicios sino tratar de comprimir gastos de forma aparente reduciendo el gasto efectivo en el coste laboral además de situar y mantener en posición de debilidad contractual a las trabajadoras y trabajadores que trabajan en estos servicios con la publicación de la ley tres barra dos mil dieciséis del siete de abril

no se asegura uno de los aspectos clave en relación a los derechos laborales como es la subrogación del personal subcontratado ni tampoco se realiza ninguna aportación a valorar la política de subcontratación y externalización en las administraciones públicas la cuestión de la subrogación bien los saben quienes pugnan por no incluirla

unas mínimas condiciones de empleo y salarios que provocan una presión a los márgenes de beneficio de las empresas subcontratadas y en este escenario qué empresas no querían acceder a contratos públicos sin embargo para aquellos contratos públicos que se sustentan en la puesta de disposición de personal y de quizá algunos medios materiales

administración qué sentido nos preguntamos tiene subcontratar estas

en esta política de privatización abierta o encubierta que suponen las subcontrataciones y externalizaciones se cruzan aspectos como la falta de eficiencia y el empeoramiento de las condiciones laborales y de los servicios prestados en el informe análisis de la contratación pública

en los países desarrollados excede del quince por ciento del pib situándose en el caso del estado español aproximadamente en el dieciocho coma cinco

de euros anuales o más de cuatro mil cien euros anuales per cápita

la cultura y prácticamente cualquier otro aspecto de la realidad económica diaria se ve afectado profundamente por que cómo cuánto cuándo y por quien

el sector público en todas sus dimensiones territoriales y en todas sus formas jurídicas pero vamos a centrarnos en lo que sucede en el ámbito de la cultura en euskadi más concretamente en la subcontratación y externalización de la actividad propia o que se pudiera realizar con medios propios y que supone incrementar los costes de supervisión de los contratos y su correcta

desde elkarrekin podemos venimos denunciando que el gobierno vasco está fomentando un modelo cultural que no hace más que generar parques temáticos de precariedad un modelo cultural del siglo veintiuno que ante los recortes presupuestarios junto a la extensión del modelo empresarial dentro de la gestión cultural pública

el derivado de la externalización de determinados servicios empezó

las audioguías la vigilancia de salas y con más incidencia aún en la relación

y la educación las empresas que prestan estos servicios copan los primeros puestos en cuantía a las adjudicaciones de contratos

públicos en euskadi porque cada vez son más los museos y centros culturales

que tuvieron en su momento o descartando desde el principio la posibilidad de contratarlo y a la vez que ciertas empresas hacen su agosto las trabajadoras que ellas subcontratan sufren las peores condiciones laborales que se puedan imaginar

o fundaciones y administraciones que gestionan estas salas y centros culturales son perfectamente conscientes de que están alentando y dando cobijo

las adjudicaciones o les dan el visto bueno y es entonces al aplicar estas políticas laborales

cuando surgen los conflictos laborales vamos a poner casos concretos uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de la nefasta gestión laboral

del museo guggenheim de bilbao donde el gobierno vasco tiene responsabilidad directa las dieciocho personas de los departamentos de educación y orientación del museo guggenheim de bilbao en plantilla de una ett se declararon en huelga para exigir una mejora salarial

las condiciones de trabajo no eran dignas en un museo que recibe dinero público entorno a unos seis millónes de euros anuales y qué hizo la dirección del museo financiado con dinero público ante las justas reivindicaciones de las trabajadoras

el cese de la relación con la ett que había llevado a cabo durante dos años la externalización de sus trabajos y la internalización del trabajo que estaban realizando sus trabajadoras lo que supuso el despido inmediato de la mayoría de estas personas

de la fundación se redujo a tres personas y las demás perdieron su empleo las tres contrataciones fueron de trabajadoras

en los últimos meses dictan que hubo venganza y represalia del museo hacia las trabajadoras por realizar la huelga que la huelga es un derecho constitucionalmente protegido esta sentencia

de la huelga ni más ni menos por ello el centro debe readmitir a las demandantes y obligó al museo a pagar una indemnización de más de seis mil euros para cada huelguista readmitida además de declarar

algo que demuestra que sus reclamaciones eran justas desde el principio y que el museo actuó de forma absolutamente irresponsable e ilegal sigamos con otro ejemplo de precariedad el museo de bellas artes de bilbao la plantilla de auxiliares de la sala

tenían unas condiciones laborales lamentables salarios de miseria inseguridad en el empleo además

por catorce pagas al año finalmente se logró

anuales este acuerdo garantizaba además el derecho de subrogación

por las instituciones vamos con otro caso las veinticinco personas que trabajan subcontratadas

sin tener garantizado su puesto de trabajo al no estar garantizada la subrogación ante los cambios de empresa adjudicataria los salarios que perciben están entorno a los ochocientos euros el centro abre los trescientos sesenta y cinco días al año

son a tiempo parcial y en los últimos ocho años se les ha congelado el sueldo hay que señalar además que el convenio colectivo que se les viene aplicando estos ocho años

ni con el servicio que desempeñan y que su aplicación ha sido absolutamente irregular

pero como ya explicamos en la interpelación de hace unas semanas

en donosti que llevan más de cien días en huelga unas condiciones de trabajo dignas que se podría solucionar si ustedes ponen de su parte

teniendo en cuenta que el consejo de administración de tabakalera está conformado por representantes de la diputación de gipuzkoa del ayuntamiento de donostia y del gobierno vasco no entendemos desde nuestro grupo parlamentario cómo no se toman medidas y por qué hasta el momento no se ha resuelto una situación de una precariedad laboral inaceptable en una infraestructura cultural

bajo su responsabilidad las trabajadoras en huelga tan solo quieren llegar a un acuerdo que ponga fin a la precariedad a la que se ven sometidas unas condiciones laborales que hacen que no puedan disfrutar de las vacaciones cuando quieran sino que se encuentran distribuidas en sus semanas de descanso propiciadas por el trabajo a turnos que realizan

neta de novecientos noventa euros por mencionar dos de las condiciones de trabajo en las que se encuentran en definitiva llevamos tiempo denunciando

impulsada por los partidos políticos que gobiernan nuestras instituciones esta externalización este modelo de generar parques temáticos de precariedad en infraestructuras culturales del siglo veintiuno tiene como consecuencias la eventualidad menores salarios y menos derechos y garantías para las trabajadoras todos estos conflictos que es la administración publica la responsable de la gestión de los mismos y el objetivo de la administración no es ofrecer un buen servicio público en buenas condiciones sino tirar a la baja la licitación del servicio sin importarles las condiciones laborales y favoreciendo oh sorpresa los intereses de las empresas adjudicatarias y estos conflictos también tienen otra cosa en común muchas veces el partido

en el poder en esas administraciones es el partido nacionalista vasco estas trabajadoras

mejores condiciones laborales y en muchos casos estas huelgas se alargan en exceso

y del gobierno vasco cuando en este caso en el de tabakalera es corresponsable porque además es miembro como ya he dicho del consejo

por ello hoy nosotras hemos traído una iniciativa y lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo y no ha sido porque no lo hayamos intentado

de fuerzas políticas una iniciativa que responde fundamentalmente a dos cuestiones la primera a que este parlamento muestre su apoyo y se manifieste en favor de las trabajadoras y se situé en favor del empleo de calidad en las infraestructuras y espacios culturales en euskadi

tener unas condiciones de trabajo dignas pedimos ante problemas concretos soluciones concretas y nos encontramos

de querer acordar la otra cuestión que planteamos en nuestra iniciativa es la de elaborar un estudio detallado sobre las externalizaciones en las infraestructuras y servicios culturales de euskadi porque

hoy aquí pero hay muchos más y a que se cumpla rigurosamente la ley tres barra dos mil dieciséis de inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública porque entendemos

las instituciones tienen que garantizar preservar y defender las condiciones laborales dignas por encima de los intereses económicos para nosotras

que pone soluciones concretas a la lista de conflictos laborales y a la expansión y normalización de la precariedad en los espacios culturales en euskadi pero nos hemos encontrado y a tiempo están ustedes de votar a favor con

por la mayor parte del resto de grupos y lamentamos que ante un problema concreto y una solución concreta que nosotras presentamos hoy ustedes decidan no hacer

es una biblioteca de creación

quiero subrayar lo de especializada en cultura contemporánea y abierta a la ciudadanía ubik más allá de los servicios imprescindibles y básicos de una biblioteca

creativa propicia interacciones conexiones y experiencias de conocimiento compartido de colaboración y de co creación propicia cultura inclusiva y transformadora y por eso es vital ubik no es solo una biblioteca no es un espacio de ocio al uso

no es un espacio para que el marco incomparable quede más bonito sino para producir experiencias que sean incomparables baina esperientzia

es un modelo de precariedad que esconde una realidad invisible

una realidad no valorada no reconocida mal pagada y muy precaria

porque el acompañamiento en la exploración en la experimentación en la generación de interacciones en la comunicación en todas esas experiencias que ofrecen estos espacios

pero requiere preparación requiere personas preparadas especializadas y con muchas competencias todas esas experiencias asociadas a esos espacios culturales requieren preparación requieren crear materiales soportes herramientas

las condiciones para la creación requiere diseño y requiere tiempos que hay que reconocer sin olvidar además que muchas de esas personas que hacen esos trabajos de mediación

los daños que generan nuestras políticas culturales tienen que reparar expectativas truncadas tienen que reparar desajustes y eso también hay que reconocerlo y valorarlo

con que todo esto lo que es un modelo digamos de vanguardia se gestiona con un modelo

bajo criterios que son totalmente capitalistas una cultura inclusiva transformadora con un modelo de gestión precario y totalmente capitalista que si algo precariza es la vida de las personas

esta imagen romántica de los y las creadoras que crean más en precariedad no me la creo creo que se puede crear

nosotras entendemos que no hay una alineación en lo que es ese intento de apostar por una cultura transformadora inclusiva con respecto a lo que es

nos decía antes larraitz ugarte que no se puede tener infraestructuras de primera

gestionando las miserias de las personas los compañeros y compañeras de ubik que vinieron aquí

ingenieros ingenieras gente con una preparación muy importante especializadas con salarios de menos de mil euros aunque como este gobierno ha empezado a valorar como muy positivos los mil euros pues a lo mejor es que se considera

este es el resultado de esa actitud proactiva

que tiene entre otros este gobierno este también es principio de realidad

también es principio de realidad también a esto hay que responder con responsabilidad nosotros lo que pedimos es que las entidades que forman parte de esos consejos de administración se alineen con ese proyecto de cultura que están impulsando

y que además hagan esa labor de mediadores y generen condiciones de vida digna que permitan crear

con gusto y con aliciente por eso proponíamos nosotras aparte de reconocer la situación que están viviendo los mediadores y las mediadoras

aparte de decir que no se pueden separar las políticas culturales de las políticas

adecuadas y dignas no se pueden separar esas políticas proponíamos que se aprobara aquí esa ley

otras formas de contratación en el desarrollo de estas políticas culturales

y de otros ámbitos por terminar diría

que si se apuesta por la cultura que sea inclusiva que sea transformadora eso está totalmente reñido con una cultura que esté mercantilizada que se aproveche digamos de la formación de la especialización y no la reconozca que no reconozca los tiempos para la creación

es una situación que se repite en otros ámbitos de la responsabilidad pública desde otros ámbitos mantenemos el mismo discurso y entendemos que la aplicación de cláusulas sociales de ir a unos criterios a una nueva cultura

para la contratación pública es indispensable para que podamos realmente abordar esos retos que se planteaban en esa misión como la que planteaba

esto es política real esa política real a la que hacía referencia la señora

ofrecen seguridad jurídica a lo mejor ofrecen seguridad jurídica pero no ofrecen de ninguna manera seguridad vital

y a todas dado cómo va la marcha del día y también el punto que hoy nos ocupa y en concreto lo ha dicho la señora

en huelga es una situación difícil es una situación que se está

en el tiempo y que a todas y a todos los que vivimos en donostia muy cerca de tabakalera o un poquito más lejos pero yo creo que a todos aquellos que estamos

comprometidos con el objeto que en principio yo creía

y nos debe ocupar por eso quiero empezar por solidarizarme y preocuparme por la situación de esos trabajadores y trabajadoras y de sus familias por el largo conflicto laboral que mantienen abierto con la empresa prestataria del servicio compartimos

en alguna de las enmiendas presentadas y además se ha dicho en la tribuna por más de una de las oradoras

uno de los principios fundamentales de las políticas de contratación pública impulsadas o promovidas por el gobierno vasco por cualquier institución pública en aquellas políticas de su competencia y responsabilidad

apostamos por ese principio manifestado creo que era en la enmienda de totalidad de eh bildu de la señora

que el gobierno vasco como igual apoyamos también en las juntas generales de gipuzkoa y pedimos a diputación foral debería de seguir manteniendo dentro de las materas de su competencia diálogo

el diálogo y la negociación oportuna entre la empresa y la representación sindical con el fin de asegurar y garantizar las condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras y trabajadores de la biblioteca ubik de tabakalera yo comparto

también por mi hija no es un parque temático tabakalera no es algo para los turistas es un esfuerzo de muchas instituciones y muchas ideologías políticas presentes en este parlamento por hacer y construir un centro contemporáneo de primer orden aquí en nuestro país y creo que se ha intentado y en muchas ocasiones se ha conseguido asimismo también comparto un centro de esa calidad sin unas condiciones laborales ajustadas para los trabajadores y las trabajadoras otra cosa es que comparta que no se haya hecho nada

miembros del consejo de administración por ejemplo el señor itxaso

para que se replantease este asunto y pudiera ajustarse las condiciones laborales mucho más dignas y ajustadas a otros servicios

la misma empresa que tiene adjudicado el servicio ubik por ejemplo es la escuela de cine que tiene unas condiciones mucho mejores

cómo hacer ese tránsito nosotros entendemos que sí se puede impulsar el diálogo y sí se pueden hacer unos pliegos que vayan dentro de esa dignificación de las condiciones laborales ajustada al servicio de primera que estoy segura que ellos están

otra cosa es que eso solo sea o pueda solucionarse mediante la aplicación de un convenio específico yo sí creo que hacen un trabajo especial

de especial relevancia en la interrelación con determinadas personas

pero también sé o es la opinión al menos del grupo socialista que lo que echamos en falta es un convenio específico no de aplicación

de la integración social porque entre otras cosas los y las integradores no sé si lo entenderían

especial para ese personal de los espacios infraestructuras culturales más allá de las bibliotecas todos estos centros que se están creando insisto

para ajustarse a esas nuevas ofertas culturales que como decía la señor kortajarena son de primer orden

cuando menos en unas condiciones dignas porque comparto con usted que crear no se crea mejor en precariedad los y las artistas tienen las mismas los mismos derechos y las mismas garantías o deberían de tenerla de desarrollar su trabajo también el que hace

y el consumidor o consumidora de cultura de hacerlo

que todas las demás eso no lo voy a cuestionar por tanto puede hacerse algo sí porque de hecho se está haciendo en alguno de los servicios

en ese sentido es por lo que yo he entendía como discrepo de la aplicación del convenio de integración sino que desde el grupo socialista apostamos por el trabajo entre aquellos a los que les corresponde y aquellas que es la representación sindical y la empresa

para un convenio territorial específico en relación a los agentes culturales que trabajan en este sector mientras tanto mientras ese diálogo y esa negociación habrá que actuar claro que habrá que actuar y se puede actuar siguiendo cumpliendo con rigor

la posición política que ella ha mantenido y que ha reiterado

no tenga un consenso político más amplio se puede resolver o se puede mejorar considerablemente

por eso no ha podido ser un acuerdo porque entendíamos lo he dicho claramente nosotros no creemos en que se deba de aplicar ese convenio ni que el problema solo sea una aplicación del convenio

los miembros del consejo de administración pueden actuar a través de la elaboración de los pliegos de condiciones para mejorar el servicio como se ha hecho con otros servicios que se prestan

únicamente a las infraestructuras culturales ni únicamente con ocasión del conflicto laboral

abrir el proceso del análisis de la externalizaciones que me parece

pero que dentro de la particularidad que ahora estamos tratando nos parecía que no cabía

ni que de las conclusiones de un informe saquemos algunos aspectos que nos ayuden a mejorar a través de esa incorporación de las clausulas sociales o a través de las mejoras de los pliegos de condiciones los servicios

de esas infraestructuras culturales porque acabaré con esto si hay alguna interpelación ya contestaré

a la aplicación de un convenio que no es pacífica la aplicación del convenio de integración social tampoco tenemos porque esperar a que patronal y sindicatos acuerden un convenio para el sector que en nuestra opinión la del partido socialista

pero sí creemos que desde el consejo de administración como se pone en la enmienda o se sugiere en la enmienda de totalidad presentada con el grupo nacionalistas vascos

puede resolverse a través de la mejora de los pliegos como se ha hecho renunciando a los aspectos económicos en favor de las condiciones laborales

insisto la misma empresa que tiene el conflicto con los y las trabajadoras de ubik

esto es lo que puedo decir creo que la iniciativa

respondía a una preocupación que también es de este parlamento

de san sebastián tenemos soluciones distintas pero creo que estamos mucho más cerca de lo que hemos demostrado a la hora de firmar una enmienda transaccional gracias eskerrik asko romero

de su proposición no de ley de que por lo que los equipamientos culturales se refiere el objetivo de la administración no es ofrecer un buen servicio público sino tirar los precios a la baja

a las trabajadoras y trabajadores de los servicios no se corresponde con la realidad

esa subcontratación que usted demoniza se da por distintas razones pudiendo ser abaratar costes una de ellas porque aquí todo el mundo ha de amoldarse a su presupuesto pero no necesariamente la única

que las administraciones consideren que necesitando el equipamiento puesto en marcha un servicio ese servicio

puede ser variada recurso este de subcontratar que por otra parte usamos todos al parecer

a su interpelación que este recurso lo usamos todos y menciono una serie de

en la que también está instalada la empresa sedena en concreto o acaso por otra parte hay que recordar quién decidió subcontratar el treinta de marzo de dos mil quince el servicio ubik de tabakalera hacemos memoria quién gobernaba en el ayuntamiento de donostia o en la diputación foral de gipuzkoa claro luego hay referencias a infraestructuras de primera y condiciones de cuarta

la cultura transformadora a políticas reales a seguridad jurídica versus seguridad vital pero es que lo que se demuestra muchas veces es que no es lo mismo predicar que dar trigo la secuencia prosigue

pongamos que por poner ejemplos concretos hablo de la biblioteca ubik de tabakalera donde el precio de licitación

es cierto que a menudo este tipo de oferta a la baja se hace a base de las diferencias de los convenios que se manejan

al carro de pájaro en mano que ya habrá tiempo de luchar por el ciento volando sin denunciar muchas veces las condiciones salariales desde un

extendiendo toda clase de sombra de sospecha sobre muchas personas

prosigue con que cuando se comienzan las legítimas reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales y salariales muy habitualmente se sigue

bloqueando la negociación colectiva bloqueando la negociación entre la empresa y los trabajadores manteniendo huelgas indefinidas con la caja de resistencia al objeto de confrontar con la administración en una estrategia denominada de contrapoder y esto no sucede únicamente en el ámbito de los trabajadores de la cultura

y para muestra un botón fíjese lo que usted decía al final de su primer turno de palabra el pasado veinte de marzo

les decía entendiendo que es una cuestión privada decía usted

creemos que hay recovecos como es el consejo de administración de tabakalera que al estar integrado por el propio consejero de cultura señor zupiria y por otros miembros que son representantes públicos hay un punto de responsabilidad contra la que sí se puede realizar algo

cuál es el recoveco estas iniciativas legislativas la interpelación y esta posterior moción con qué objeto bueno pues ya lo dice usted la de realizar algo contra ello

de cláusulas sociales en la contratación pública que nosotros presumimos que ya se hace y que pide además un estudio detallado sobre las externalizaciones con un rosario de detalles a realizar

y aquí los miembros de este parlamento se supone que venimos a parlamentar es decir a hablar

y a tratar de dirimir las diferencias que podemos encontrar desde la base de nuestros argumentos y de nuestras ideologías y hoy

y tratar de explicar con palabras sencillas por qué desde el grupo parlamentario de los populares vascos rechazamos la iniciativa que la señora garcía ha subido al comienzo de este punto del orden del día a explicar profusa y detalladamente nosotros estamos en contra señora garcía de su iniciativa

pero también le debo advertir que

nos ha presentado y ha sometido a debate muchas veces con las palabras queremos decir cosas pero lo cierto es que las palabras dicen lo que dicen y usted ha terminado su intervención diciéndonos que propone soluciones concretas a problemas concretos

cuando en su iniciativa no se habla para nada de ellos luego eso no son soluciones concretas

nos pide el respaldo a una iniciativa donde no se habla de ellos nosotros desde nuestro grupo hace escasos días mostramos el apoyo a los trabajadores

no a los trabajadores nosotros dimos públicamente nuestro respaldo porque ya anteriormente el portavoz de mi grupo se había reunido con ellos y les había mostrado

pero en su iniciativa no hay nada que permita ayudar al problema que esos trabajadores tienen en san sebastián y que el otro día ya nos explicaron en comisión

respetamos claramente y exigimos que se defienda y se respete el derecho de huelga de todos los trabajadores de todos los asalariados

y no muy claramente definido en nuestra legislación y a mí me gustaría que estuviera mucho mejor regulado pero ese no es el debate hoy y nosotros defendemos

individual y colectivo del derecho a la huelga de los trabajadores ahora bien usted nos propone de una manera discriminatoria que apoyemos el derecho

las trabajadoras de los espacios e infraestructuras culturales cuando está dejando de lado a la mitad de esos trabajadores

dice lo que dice y aquí aprobamos textos que quedan recogidos en el diario de sesiones y en esos textos no se ve la intención de las palabras

las palabras señora garcía esa es la realidad a mí me gusta mucho la ironía y me gusta mucho la ironía escrita pero me parece muy complicado tratar de jugar con el sentido de las palabras con una intención sea cual sea esa intención realmente a la hora de interpretar lo que se recoge en las resoluciones o lo que se recoge en los contratos o lo que se recoge en las leyes a donde hay que ir es a la literalidad de las palabras y la literalidad de las palabras no tiene nada que ver con lo que usted nos ha dicho hoy en esta tribuna

apoyar directamente a todas las personas que trabajando en espacios o infraestructuras socioculturales están ejerciendo su derecho

un derecho por otra parte que es la última ratio que tienen los trabajadores es el último instrumento que les queda a los trabajadores es el más desagradable y por eso cuando un trabajador decide ir a por eso optar por esa posibilidad sufre las consecuencias inmediatas de dejar de trabajar que es

dejar de percibir las cotizaciones a las que está obligado el empresario y dejar de tener toda la que el derecho laboral le da algo que algunos y algunas trabajadoras últimamente y concretamente en esta cámara no han

nos insta por tanto a que respaldemos unánimemente a todos aquellos trabajadores de este colectivo concreto que están en huelga yo no lo puedo hacer porque muchos de esos trabajadores

y lo hacen en perjuicio de otros tendríamos que juzgar cada caso de esos colectivos de esas empresas que están en huelga cuyos trabajadores están en huelga para poder decidir si les respaldamos o no les respaldamos no nos pida

tan genérica de respaldemos a todos los trabajadores que están en huelga porque yo no puedo compartir las intenciones y los efectos que esos trabajadores con el ejercicio individual de su derecho están ejerciendo los efectos que tienen en terceras personas en el resto de los ciudadanos por otra parte nos pide que al gobierno a que cumpla al gobierno vasco a que cumpla

puedo apoyar en este caso en la enmienda de eh bildu nos está diciendo la señora kortajarena ya que el pisuerga pasa por valladolid que aprovechemos y

ha sido mi compañera la señora llanos la que hace escasos minutos le ha explicado por qué no podemos apoyar este testo porque entendemos que no es enmendable que es infumable que está lleno de errores

podamos debatir en otros momentos sobre textos que efectivamente creamos que sí que te pueden llegar a buen término en el debate y en la tramitación

estudio sobre cómo se han subcontratado todos estos servicios que se prestan

inmediatamente para que sea la administración la que preste directamente el servicio y yo en eso no estoy de acuerdo mire le voy a dar

porque por eficacia y eficiencia de la administración que es como tiene que trabajar día a día la administración a la hora de prestar los servicios en muchas ocasiones la prestación indirecta es decir a través de subcontrataciones de los servicios a los ciudadanos consigue dos cosas uno un ahorro para los ciudadanos y dos sobre todo una mejora infinita en el servicio hay servicios que no pero hay muchos servicios que sí

si fruto de este estudio que está usted pidiendo en estos momentos la administración pública

de gipuzkoa y el gobierno vasco decidieran prestar directamente el servicio todos los trabajadores de la biblioteca ubik

su trabajo y nosotros no queremos eso y como no queremos eso tampoco vamos a apoyar

el peso del gobierno vasco porque nosotros no creemos que haya que instar al gobierno vasco a que vuelva otra vez a tratar de solucionar pese a que de la intervenciones de los miembros del gobierno en la mayoría de la ocasiones

no es esa y ya se ha oído en este propio debate casos en los que precisamente esa actitud del gobierno y esa

lo que hace es enquistarlos más y conseguir que no vayan a buen término les voy a poner el ejemplo claro que tenemos encima de la mesa

la huelga de los trabajadores de la educación concertada donde el papel del gobierno

de nada respetamos a esos profesores en huelga

de su iniciativa genérica bajar a la solución de un problema concreto del que usted no ha hablado lo que no entiendo siquiera es por qué la mesa ha admitido
a trámite una enmienda que no tiene nada que ver sobre la iniciática inicialmente planteada muchas gracias eskerrik asko

porque a ustedes les gusta salir aquí a explicarme a mí lo que digo o lo que quiero decir o lo que

y al señor urrutia cosa que agradezco que no hayan hecho

pero le explico personas trabajadoras personas trabajadoras y espero que se incluya usted

y que se sienta incluido y que no se sienta por eso mal cuando digo trabajadoras sí personas trabajadoras señor arbulo dicho todo esto

resulta que le voy a explicar a esta señora lo que ha querido decir en vez de hablar de lo que esta señora quiere decir y hablar de las trabajadoras

y yo la verdad que le agradezco pero no vale no vale porque no estamos hablando ni de personas trabajadoras ni de usted ni de mí estamos hablando

que están en huelga con unas condiciones laborales en absoluta precariedad y creo que no está el tema para andar hablando de cuestiones técnicas que no van a ningún sitio

que es una enmienda general que no habla

pues mire yo que soy más de explicar lo que yo escribo le diré que aprobando

realmente se apoya a las trabajadoras de ubik y si usted lee bien el principio

apoyo a las trabajadoras que se encuentran en huelga en espacios culturales blanco y en botella y usted quiere decir lo contrario pues dígalo estupendo pero yo sé perfectamente

es grave porque de verdad es una falta de respeto a las trabajadoras hablar de la huelga no como un derecho fundamental sino como el objeto de confrontación

creo que estamos hablando de un derecho fundamental y creo que poner en duda el derecho a la huelga no le ayuda pero claro estamos hablando es mejor hablar de la iniciativa es mejor además usted ha hablado de la propuesta de transacción de que vuelve a no tener nada que ver la propuesta de transacción que yo les envíe con la iniciativa

llevaba sus aportaciones y hacía referencia concreta

porque entendemos que aprobando esa iniciativa se crea un precedente para que no exista o para que en conflictos futuros

no haya como ha habido hasta ahora una inacción y una falta de respeto hacia las trabajadoras porque hablaba usted de precarización

y salgamos aquí a hablar o a intentar poner en duda el derecho a huelga que creo que ha sido cuanto menos un comentario desafortunado porque mire

cuál es el resquicio es que hablamos la solución

no mucho más de una institución que tiene un presupuesto aprobado para este año de seis millónes de euros un resquicio

que no es más que eso nosotras en la iniciativa

y de adelantarnos a que las condiciones laborales en un futuro en los espacios culturales no sean solo como la de ubik sino la de otros ejemplos que he puesto y que desgraciadamente

porque las trabajadoras señor arbulo las personas trabajadoras se han movilizado y han conseguido mejorar sus condiciones y decía usted señora romero o igual le he entendido mal porque siempre me pasa que cada vez que salgo usted me entiende mal

pero se lo voy a explicar hablábamos de parque temático de la precariedad no hablando específicamente de espacios culturales

nos parecían un parque temático de la precariedad a eso nos referíamos y en cuanto a lo que ha dicho la señora

pues estamos de acuerdo en la mayor parte de las cuestiones que usted ha puesto aquí

sobre el debate hablando y además ya lo habíamos hecho

el modelo cultural que queremos evidentemente una cultura de calidad no va a ningún sitio si las personas que están dentro las trabajadoras no tienen unas condiciones de trabajo y evidentemente hablamos de personas muy preparadas que están cobrando y están en unas condiciones muy precarias y ante esta situación lo que hemos intentado es poner una solución concreta y partiendo de un problema concreto hemos puesto soluciones generales porque hay más de un caso concreto y eso incluye a las trabajadoras de ubik y a otras trabajadoras en infraestructuras y espacios culturales

estupendo pero no salgan aquí a explicarme lo que yo quiero decir salgan a decir lo que ustedes quieran decir

es una solución a algo concreto a partir de aquí ustedes sabrán eskerrik asko eskerrik asko garcía

berriz ere y yo voy a empezar mi intervención reiterando mi solidaridad con las trabajadoras con las trabajadoras de ubik

en los que están viviendo situaciones de precariedad y me dirijo a ellas

refiriéndome a todas las personas que están trabajando en esos espacios culturales eta ni bat nator la señora

de demostrar nuestra solidaridad y apoyar ese tipo de procesos cuando se dan esos conflictos creo que es una actitud diferente a la que ha mostrado aquí el señor urrutia

para la situación que están viviendo las trabajadoras de ubik pero también hay que buscar y establecer condiciones

y para que ese modelo de precariedad que se está instalando y que está ya instalado se pueda revertir y para que esos criterios mercantilistas

están siendo los dominantes digamos en la contratación pública puedan verse revertidos por otra serie de condiciones y porque tengamos un modelo de contratación pública que permita

se puedan dar en condiciones de dignidad en condiciones en los que se respeten

relaciones laborales adecuadas que se apliquen digamos esos convenios de referencia que se establezcan en cada caso pero que también vigilen digamos

de los contratos que se sacan a licitación y que establezcan las condiciones en esas licitaciones que sean adecuadas y que se ajusten con el objeto

de la actuación que se quiere contratar y si estamos hablando en este caso concreto de cultura vanguardista si estamos hablando de cultura transformadora si estamos hablando de cultura inclusiva

esto requiere de personas que tengan perfiles capacitados formados y preparados para atender ese tipo de experiencias que se dan

en esos pliegos de licitación pero también hay que vigilar las condiciones de ejecución porque esas empresas hay muchas de las empresas que operan en este ámbito de la industria cultural y que operan en este tipo de licitaciones

de estas infraestructuras culturales que en ocasiones por el meter el morro en algunas infraestructuras

bastante difíciles de cumplir y a esas empresas también hay que exigirles que cumplan

sí gracias señora presidenta si me permite desde el escaño yo ya

he oído que ha dicho parque temático en general con determinadas infraestructuras culturales y yo que conozco aquella que nos referimos

no lo consideramos así porque hemos visto cuáles son las prestaciones que tiene tabakalera y que se han trabajado y que no se quiera hacer nada se lo he dicho desde luego desde el grupo socialista no es que

dicho es que lo que se dijo se hizo lo que se dijo se hizo porque se intervino por parte del diputado de cultura de la diputación foral de gipuzkoa y es más he dicho que se pude hacer

económicas en favor de la dignificación de determinadas condiciones laborales puede conseguirse claro que esto es a corto plazo y para solventar

usted tiene una propuesta nosotros tenemos otra nosotros creemos que con la ley de contratos del estado no solo

que se cumplan o no creemos que también se establece como criterio para la adjudicación por fin el que se den o no esas condiciones y nos parece que junto con la ley vasca es un paso importantísimo en favor de esa dignificación

de las condiciones laborales de todos los trabajadores y las trabajadoras por no decir

elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores que acabe con la precarización actual

última reforma laboral y yo creo que en el camino

esto se puede solucionar porque quien lo está pasando mal no somos nosotras y nosotros sino los trabajadores y las trabajadoras de ubik y tiene solución por lo tanto la dirección junto al consejo de administración

pueden poner solución a esto como se ha puesto en el pliego de condiciones de la escuela

legebiltzar buru andrea señor de arbulo

de omnipotencia por nuestra parte mire no voy a entrar no voy a entrar

pero yo le diría que ninguna y dice que es que no tenía nada que ver

señora garcía y que no sabe usted cómo la mesa ha aceptado a trámite esta enmienda mire a modo de recordatorio surge de una interpelación que precisamente hablaba tanto del caso particular de ubik de tabakalera

como de un aspecto más general que

hacer yo creo que se estipulaba un criterio más general sobre una precarización de los equipamientos culturales y

que tuvimos todavía hace diez días en la comisión de trabajo y justicia donde precisamente hablamos del tema de ubik creo que

han hablado del tema de ubik no creo que estamos tan desubicados hombre señora garcía mire yo creo que en ningún momento me he lanzado a interpretar lo que usted ha dicho o ha querido decir yo simplemente le he dicho

tres cosas una que para nosotros esa imagen que quiere usted dar de que

los precios a la baja etcétera etcétera no se corresponde con la realidad ni con la consecuencia real de los hechos y la siguiente cosa que le he querido manifestar es cuál es nuestra posición que es una posición hombre que yo creo que era conocida verdad

el señor consejero la dejó bastante clara el día de la interpelación

y tenga por claro una cosa claro que el derecho de huelga es un derecho fundamental o sea realmente me ofende

derecho de huelga es un derecho fundamental yo mire usted

no no así de claro lo que digo lo que he dicho y he hecho creo que he hecho un recorrido por cómo se utiliza

bloqueando la negociación colectiva bloqueando los acuerdos entre empresas y trabajadores para para confrontar con la administración y esto es un hecho

más de lo mismo y que realmente había introducido algo de bildu y algo realmente trasformado de lo que nosotros habíamos propuesto en el tema

aceptable y esto de que a mí me gusta la precarización mire

a mí esto de que me gusta la precarización no de la misma manera que no reconoce usted un solo derecho fundamental más que yo

tenga usted por seguro que a mí la precarización no me hace ni pizca de gracia pero vamos a casos concretos vamos a casos concretos usted hablaba del museo guggenheim y de otro caso que

pero hablemos de ubik porque usted aquí se ha dicho soluciones concretas a problemas concretos soluciones concretas

al dejar la huelga más un dieciocho por ciento más posterior para poder incluirlo en futuras licitaciones y le recuerdo lo que dijo el señor consejero dijo

hitz hauetatik usted decía señora garcía

ubik reclama soluciones y diálogo el orden es el contrario diálogo que traerá soluciones y luego ha hecho un comentario también que decía todo esto tiene en común que el responsable de esta subcontratación es la administración pública y al mismo tiempo el partido que gobierna en todas esas administraciones

hau da azkena me temo que su problema está más

que en la propia administración que forma parte común de esas subcontrataciones eskerrik asko eskerrik asko

yo le he dicho desde un principio señora garcía que carezco de la capacidad para

simplemente me he ceñido a lo que usted nos ha dicho hoy aquí y lo que usted nos dice hoy aquí con lo que preparamos todos los debates es el texto de la iniciativa los textos vienen muy bien que estén escritos si no no serían textos lógicamente viene muy bien que estén escritos porque se pueden releer usted no habla de personas trabajadoras usted de trabajadoras y no es lo mismo y usted me reconocerá que no ha mencionado personas trabajadoras en ningún punto de su iniciativa no aparece usted

y eso tiene que llevarnos a interpretar lo que usted ha querido decir caray escriba las cosas claras y así no nos perdemos en las interpretaciones que es mucho más sencillo soluciones concretas a problemas concretos dónde habla usted de los trabajadores personas trabajadoras o trabajadoras de la biblioteca

en ningún sitio en ningún sitio nosotros respaldamos a esas personas por supuesto lo hemos hecho públicamente y en privado pero es que usted

de ellos y es más si quería hablar de ellos haberlo puesto porque entonces entenderíamos todos claramente qué es lo que ha venido aquí a decirnos

y le insisto y se lo he repetido antes usted a un problema general que no concreto pone una solución que sea que es que la administración por favor señora garcía no me diga que no léase lo que escribe

que sea la administración pública quien preste directamente ese servicio y eso significa de inmediato

ubik de otros de los centros que están dentro del edificio de tabakalera y de muchos espacios e infraestructuras socioculturales se irían a la calle eso es lo que está pidiendo en su iniciativa en el último párrafo literalmente lo que ha dicho si usted no dice lo que pone y quiere decir otra cosa por favor escriba lo que realmente quiere porque usted de esos trabajadores en ningún momento y por eso precisamente yo le he dicho a los grupos que sustentan al gobierno que no entiendo por qué se les ha admitido si la iniciativa original no habla

que habla de un colectivo concreto cuando es un asunto diferente de la iniciativa que ha dado origen al mismo y le reitero yo no puedo no puedo en ningún momento respaldar que se inste por uno o por otro de los grupos o por tres de los grupos de la cámara a que sea el gobierno

está subcontratada por la administración pero esos trabajadores y esa empresa tienen unos mecanismos para solucionar y dirimir sus conflictos y si no

foral de gipuzkoa o el ayuntamiento de san sebastián yo le digo por qué no quiero que intervenga el gobierno el mayor empleador de euskadi

señor lehendakari es el responsable de esa empresa porque de alguna manera o para equipararlo a las empresas privadas dirige el consejo preside el consejo de administración

venimos y oímos continuamente a los representantes de esos trabajadores que no están en absoluto contentos con la gestión de personal que se está haciendo en esta gran empresa la primera empresa en número de trabajadores del país vasco a quien tiene esos criterios le pedimos que intermedie para qué

a las gallinas y esa no es la solución y por eso no vamos a poder apoyar ni su iniciativa ni la de los grupos que sustentan al gobierno de la misma manera que a la señora kortajarena
le he explicado por qué no podemos sostener ni apoyar ni votar ni abstenernos en su enmienda muchas gracias eskerrik asko